y que tiene como objetivo principal que este parlamento muestre su respaldo unánime e inequívoco al turno de oficio y al derecho a la asistencia jurídica gratuita que realizan abogados y procuradores a aquellas personas sin medios económicos que precisan acudir a los tribunales

no se nos escapa que el beneficio de justicia gratuita es la única herramienta que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a la justicia como servicio público y esencial derecho que se encuentra recogido en la carta magna cuando proclama en su artículo veinticuatro que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de esos derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse

promovemos desde los grupos nacionalista y socialista el respaldo de esta cámara a este servicio público esencial ante el desaguisado que se ha creado por la dirección general de tributos
que realizó una nefasta y equivocada interpretación del sistema español de asistencia jurídica gratuita mesedez isiltasuna

lo realizaba supuestamente de una sentencia que dictaba el tribunal de justicia de la unión europea que se pronunciaba al respecto de la sujeción al impuesto sobre el valor añadido

que en ningún caso solamente hay que compararlos es asimilable al establecido en el estado español y que está regulado por la ley uno barra mil novecientos noventa y seis

a asociaciones de consumidores y usuarios a colegios profesionales y a abogados el ministerio de economía provocaba un incendio generando un problema donde no lo había

y del beneficio de justicia gratuita para acudir a los tribunales en defensa de sus intereses o para la búsqueda de sus derechos la dirección general de tributos

la naturaleza jurídica del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita en españa eliminando de un plumazo su carácter de obligatorio y gratuito que nadie

dejaban de estar exentos y que pasaban a estar sujetos al veintiuno por ciento del impuesto sobre el valor añadido una auténtica locura no solo por las maneras en las que se decidía unilateralmente y a través de una consulta tributaria sino por el fondo porque se modificaban las características esenciales de un servicio público

ahora para arreglar este desaguisado se han de proponer medidas que podíamos calificar como medidas apagafuegos la primera

con su homólogo de economía el señor montero pues dejar en suspenso la interpretación irracional que ha realizado la dirección general de tributos

que es modificar la ley uno barra mil novecientos noventa y seis de asistencia jurídica gratuita para que esta ley diga de una manera más clara y contundente

esta ley esto es que se trata de un servicio público gratuito y obligatorio en el que abogados y procuradores cobran una indemnización que no sus honorarios de la administración pública previamente fijada por esta por el servicio que prestan dentro del turno de oficio

que no debía estar sujeta al iva y que tampoco estará en el futuro sujeta

sé que algún grupo me podrá decir que por qué hemos mantenido esta proposición dado que

está en ello que hace dos días se ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley

dice y que por qué no hemos retirado la iniciativa yo les diría que hay dos motivos fundamentales uno porque creemos oportuno y necesario que el parlamento vasco respalde

como un servicio público necesario para el ejercicio del derecho constitucional de tutela judicial efectiva que tienen derecho todos los españoles y porque tras la intervenciones que pudimos leer en el diario de sesiones de los grupos en el congreso

para apagar el incendio que provocó el señor montoro y que otros elementos a debate y que se expusieron el pasado miércoles en el congreso por diferentes grupos

de las prestaciones del servicio que abogados y procuradores realizan en el turno de oficio en asistencia jurídica gratuita de nuestra proposición original

manteniendo los objetivos que les acabo de relatar pero que mejora

presentamos yo creo que no es necesario que me extienda más creo que todos los grupos estamos en el apoyo al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita

el pasado veintiocho de febrero por los grupos nacionalista y socialistas a fin de instar al gobierno español y a las cortes generales

en este caso en un ataque innecesario al turno de oficio y a la justicia gratuita y por ende a la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva a través de un cambio radical de criterio en relación a la fiscalidad del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita una vez más

el gobierno del partido popular en este caso de la mano del ministro señor montoro y con una clara intencionalidad recaudatoria

sobre esta materia y como luego veremos para llegar meses después tras protestas descontento y movilizaciones

algo que se está convirtiendo en habitual esta misma semana hemos hablado también en la comisión de trabajo y justicia de la institución de registro civil y sus devenires

y ahora perdida la mayoría absoluta es necesario dialogar negociar y acordar lo cual creemos muy positivo

a través de una resolución de la dirección general de tributos de que las actuaciones de los profesionales designados de oficio para la defensa de los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita

al considerar que estaban prestadas dichas actuaciones con carácter obligatorio y gratuito siendo lo abonado

una subvención pero no retribuciones propiamente dichas alegia hogeita hamar doako asistentzia juridikoa bermea izan dela baliabide ekonomiko gutxien dituzten pertsonentzat en una reciente consulta vinculante del veinticinco de enero de este año la misma dirección general de tributos cambió este criterio

y declaró que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita al amparo de la ley uno barra mil novecientos noventa y seis

que estos servicios se realizan a titulo oneroso horrek konfusio eta alarma nabarmena sortu du sektorean

se pretendía sustentar en una sentencia de julio de dos mil dieciséis del tribunal de justicia de la unión europea que resolvía una cuestión prejudicial planteada por el tribunal constitucional belga y que estimaba que esta prestación de servicios en bélgica era voluntaria y sujeta a remuneración es decir que estos servicios

sentencia europea por tanto que se basaba en el sistema de justicia gratuita belga de naturaleza totalmente distinta al modelo público español

como decíamos este cambio de criterio radical ha causado incertidumbre malestar y preocupación entre los profesionales afectados eta horregatik beste behin ere

el consejo general de la abogacía español las asociaciones de usuarios y consumidores

se han presentado en el congreso de los diputados y esta pnl que debatimos en esta cámara y las comunidades autónomas en la última conferencia sectorial de justicia el veintidós de febrero los responsables de todas las comunidades autónomas presentes se mostraron partidarios de la suspensión

y ahora lógicamente tiene que resolver el problema que el mismo crea y de manera totalmente

la justicia gratuita es un servicio público esencial para garantizar el derecho constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva de quienes carecen recursos para litigar y partiendo del mandato del artículo ciento diecinueve de la constitución española se organiza

que trabajan las veinticuatro horas del día los trescientos veinticinco días del año para garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía euskadin gaur egun

edozein izanik ere beren baliabide ekonomikoak edo kalte beratasun egoera basándonos en el criterio seguido desde mil novecientos ochenta y seis y lo dispuesto en la actual ley del impuesto del valor añadido de mil novecientos noventa y dos entendemos que los servicios de defensa y representación

para el beneficiario y obligatorios para el sujeto pasivo y por tanto no están sujetos

determina que el turno de oficio no tiene carácter voluntario y que la compensación a los letrados y procuradores no tiene naturaleza retributiva por tanto

antes y ahora es obligatorio en virtud de las normas jurídicas vigentes y gratuito dado que el beneficiario

y las cantidades que perciben estos profesionales por la prestación de este servicio

y que no se pueden negociar ni modificar y se alejan de los precios de mercado en definitiva que no se trata de una remuneración ni del pago de los servicios prestados sino de una subvención tal y como establece el artículo treinta y siete de la ley de asistencia jurídica gratuita lo que se recibe por turno de oficio es una subvención y como tal el artículo setenta y ocho de la ley del iva

al irpf de prevalecer el discutido cambio llegaríamos al absurdo de que el iva debería ser abonado por las administraciones públicas es decir que la propia administración el ministerio de justica o la comunidad autónoma con competencias transferidas debería de asumir la cuota del iva con lo que ese veintiuno por ciento de iva finalmente

a la asistencia jurídica gratuita pudiendo perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos así como también

en una clara e innegable función social altruista y vocacional en el caso de euskadi supondrían algo más de tres millónes de euros cantidades que se habrían tenido que añadir a los presupuestos para sufragar los servicios prestados por los abogados y procuradores del turno de oficio horregatik guztiagatik

instamos a las cortes generales y al gobierno de españa adoptar de manera inmediata las actuaciones necesarias para que los servicios prestados por abogados y procuradores

estén libres del iva manteniendo el criterio consolidado de que las cantidades

bien del estado o de las comunidades autónomas no tiene carácter de retribución o compensación tal y como recoge el artículo treinta y siete

gratuita sabemos que está en trámite una proposición de ley en el congreso de los diputados que se está tramitando por la vía de urgencia y por lectura única

que tuvieron lugar el pasado martes en la toma de consideración creemos necesario traer a debate

para tratar de solucionar un problema hasta ahora inexistente no genere otros nuevos problemas amaitzeko agradecer la predisposición a llegar a un acuerdo de la señora goirizelaia

desde nuestro punto de vista es una o es la última oportunidad que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas tienen normalmente las personas más desfavorecidas para acudir a la justicia y normalmente todas estas personas que utilizan este turno

o este derecho a la justicia gratuita lo hacen porque creen para solucionar sus problemas algunos muy importantes la última vía que tienen es acudir a los tribunales de justicia horregatik guk uste dugu

todavía ninguna preocupación sobre los problemas que traía la inmigración los colegios de abogados plantearon comisiones y plantearon asistencia

cuando era grave gravísimo exactamente igual que ahora pero todavía no se trataba igual la violencia que sufrimos las mujeres los colegios de abogados también plantearon y los colegios de procuradores turnos de asistencia y turnos de oficio en relación con estas cuestiones es decir

está la esencia de la justicia gratuita y del turno de oficio

de estas decisiones que tomaron los colegios profesionales fue la ley del año mil novecientos noventa y seis en la que se reguló

de oficio y de justicia gratuita y sí que quiero dar un dato que me parece importante y me parece relevante la justicia gratuita decía yo antes que no era cara y que era una inversión es que no cuesta tanto dinero a los ciudadanos y a las ciudadanas cuesta más o menos cinco euros al año a cada ciudadano y a cada ciudadana y cobran los profesionales

todo el turno de oficio o la asistencia gratuita que llevan a cabo pero es que además el abogado o la abogada que hace este servicio también tributa porque está sujeto al irpf es decir

no se paga nada sí se paga no es que no se quiera o se quiera dejar de pagar lo que corresponda no lo que se plantea es un debate en otros términos diferentes porque sí se abona el irpf zer gertatu da hemen

gaude qué ha pasado aquí pues que el estado español utilizando una sentencia que se ha dictado por un tribunal europeo ha pretendido aplicar eso y hacer una modificación de lo que ya estaba en vigor y aquí pasa como en otros muchos momentos y en otros muchos aspectos que sucede en cuestión de las transferencias y las cuestiones que tenemos

a pesar de que este turno de justicia gratuita y de oficio se paga a través de los presupuestos de justicia del departamento de justicia el estado español si modifica la ley que puedo hacerlo

la ley del año mil novecientos noventa y seis puede modificar también algunos aspectos de esta situación a pesar de lo que tenemos volvemos a tener otra vez el problema que aquí nosotras

que hay que tener un poder judicial hay que tener

para poder decidir también sobre estas cuestiones porque si no tenemos que instar al gobierno del estado español tenemos que instar al congreso de los diputados a que modifiquen esta cuestión a que acuerden sobre esta cuestión que nos afecta a las personas a las

y que además se paga a través de fondos del departamento de justicia proposamen honekin guk zer nahi dugu

el que no se tramita conforme a los parámetros de la justicia gratuita y esto qué quiere decir

esto la persona no recibe las ayudas y el abogado o la abogada se quedan sin percibir y el procurador o la procuradora se quedan sin percibir esas cantidades eso también es un tema importante eso también es un tema que tendríamos que tratar eso es un tema que creo que podemos llevar adelante a través del acuerdo y el diálogo también entre todos los grupos de esta cámara y sobre todo con el departamento de justicia que es al final quien va a tener que hacer

gracias señora presidenta lehendakari miembros del gobierno señorías buenos días a todos ya cuando se ha planteado esta iniciativa se ha argumentado y creo que claramente que efectivamente el transcurso el devenir de los hechos desde que se planteó hasta que comenzamos con este primer punto

ya los medios y las soluciones a las que se insta en el acuerdo que vamos a apoyar yo creo que todos los grupos de esta cámara ya están puestas en marcha y el debate ya

no de manera gratuita como se ha dicho aquí por parte del ministerio de economía por parte del señor montoro al que se ha citado

particular ni una decisión de gobierno el considerar que las retribuciones que se perciben por prestar el servicio

si es que sí ha sido cuestionado el sistema de alguna manera hubo un ciudadano que planteó una consulta vinculante a la dirección general de tributos

aplicando los criterios de las últimas sentencias la del caso francés y la del caso belga que se han dictado sobre la sujeción o no a iva de los turnos de oficio o del sistema de justicia gratuita que se lleva a cabo en estos dos países en bélgica y en francia ha entendido que efectivamente conforme a la redacción

sí debieran estar sujetos a iva porque en esa ley no se habla en ningún caso de indemnizaciones

en esa ley se dice claramente que son retribuciones y compensaciones por el servicio que se presta

con las interpretaciones que los tribunales de la unión europea han dado recientemente en las dos

sí que se entiende que tienen que estar sujetas a iva luego el sistema sí que estaba cuestionado inmediatamente

tenemos la resolución de la misma en enero de este mismo año dos mil diecisiete todos los colegios de abogados y el consejo general de la abogacía española

y a todos los políticos a que pongamos la solución encima de la mesa y la solución ya se ha debatido este martes en el congreso de los diputados apoyado por el grupo socialista y por el grupo popular una solución por otra parte que ha sido consultada con el ministerio de justicia con el ministerio de hacienda y administración pública y sobre todo con el consejo general de la abogacía española luego la solución

dentro de este debate ya está en marcha ya se ha debatido este pasado martes y por lo tanto las cantidades que los profesionales que trabajan y colaboran con el beneficio de la justicia gratuita y los turnos de oficio de los colegios de abogados no van a estar sujetas esa decisión de la dirección general de tributos ya está suspendida por lo tanto nosotros vamos a apoyar este acuerdo al que se va a llegar hoy en esta cámara porque nos sirve para llegar a ensalzar apoyar y elogiar la labor que los profesionales abogados y procuradores y los profesionales los trabajadores de los colegios de abogados hacen en pro del beneficio de la justicia gratuita reconocido en la ley uno barra noventa y seis que desarrolla el precepto constitucional que dice que aquellos

en nuestro país por lo tanto si ya está suspendida la decisión de la dirección general de tributos si ya apoyamos a los colegios de abogados y procuradores que han sido consultados y que apoyan el proyecto de ley que se está tramitando en el congreso de los diputados en este momento entiendo que todos los puntos que se recogen en el acuerdo que vamos a apoyar hoy ya están solucionados ya están puesto en marcha y efectivamente quizá necesario este debate hoy en esta cámara salvo por dos cuestiones la primera el punto primero efectivamente ensalzar la labor de todos los profesionales que colaboran con el beneficio de la justicia gratuita

a esos profesionales porque soy uno de ellos y quedaría bastante feo que me pusiera flores en esta tribuna como sé que también colaboran y trabajan o han trabajado en otros periodos de su carrera profesional muchos de los que hoy se sientan

esos profesionales vean correctamente retribuidas o indemnizadas las prestaciones que llevan a cabo

a que se mejoren los baremos de los colegios de abogados para que la partida de los catorce millónes que tiene los presupuestos de esta cámara aprobados

indemnización a todos los profesionales que colaboran con ello y fue precisamente por esta razón por la que le preguntamos cuando la señora consejera presentó los presupuestos de la comunidad para este ejercicio dos mil diecisiete porque nos sorprendió que habiendo quedado muy claro por parte tanto del ministro de hacienda como por parte del ministro de justicia que nunca iban a ser ni los profesionales

quienes en ese momento se tenían que hacer cargo del iva sino que iban a ser las propias administraciones públicas

fue muy clara porque ella tenía más información que nosotros humildes parlamentarios porque nos dijo que nunca se iba a llevar a cabo esa tributación en el turno

presupuestaria por lo tanto lo que le instamos es a que en el cumplimiento de ese punto cuarto

y sea digna la indemnización que los profesionales que colaboran con ella reciban por el trabajo

que realizan muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

la verdad es que cuando la parlamentaria alexia castelo y la parlamentaria jone goirizelaia nos plantearon este tema nos quedamos un poco sorprendidos porque

por qué por qué se encarece un derecho será

será de nueva una aplicación técnica para quebrar un derecho fundamental

gratuita nosotros creemos que tiene que ver con una conciencia política y clave de derechos civiles muy pequeña

tanto por parte del ministerio de justicia como por parte del ministerio de economía

y en esa línea nosotros no tenemos ningún inconveniente al revés

la proposición no de ley que socialistas vascos y el partido nacionalista vasco han puesto en marcha y apoyan bildu y ahora nos informamos también que el partido popular elkarrekin podemos está a favor del derecho a la justicia gratuita

el derecho a la asistencia jurídica gratuita de aquellas personas

acceso a una defensa adecuada de sus problemas con la justicia dos apoyamos las medidas

para la gestión eficaz de dicho derecho ciudadano amparado por múltiples pactos y convenios internacionales

de diez de enero de asistencia jurídica gratuita tres no podemos comprender la aplicación y el encarecimiento de la prestación decidido por la dirección general de tributos

al derecho a la asistencia jurídica gratuita las actuaciones de los servicios prestados por abogados y procuradores y por jurados y por notarios y por todo el proceso penal que es gratuito para aquellas personas que lo necesitan

garantista y deben continuar exentos de iva de qué estamos hablando estamos hablando de que cerca de ochocientos mil personas que en el marco del estado español en los últimos años acceden a la justicia gratuita

se han beneficiado de este derecho en euskadi en el dos mil dieciséis

el gobierno vasco que tiene transferida esa gestión ha empleado catorce coma cinco millónes en el dos mil dieciséis a esta prestación

todavía prestación escasa para la necesidad de incentivar la garantía de este derecho para los abogados abogadas procuradores y procuradoras veinticinco mil personas en el año dos mil dieciséis de las cuales

que le han atendido quince profesionales en los tres territorios por ahora no tenemos más que decir nada más que

dos breves comentarios más uno merecería la pena por parte de la consejería de justicia y de trabajo de nuestro gobierno hacer un esfuerzo

que contribuyen a la garantía de este derecho a lo largo y ancho de nuestra tierra de euskadi para aquellas personas

como dato curioso ha aumentado un veinte por ciento del año anterior al año dos mil dieciséis segundo esa mejora de la subvención en forma de asignación tanto a los abogados abogadas y y procuradoras tendrían que ampliarse a las condiciones materiales del ejercicio del derecho estoy hablando de condiciones de intimidad condiciones de confort

penal y la asistencia de los abogados y abogadas de forma más eficaz y más confortable y por último recordar que

como cualquiera del mercado que contrata a cualquier persona por lo tanto sería muy interesante que las especializaciones que

este derecho se planteen haya accesibilidad suficiente y adecuada para que como en el caso de las mujeres

quince profesionales aproximadamente se encargan en concreto de todo el mundo de las agresiones machistas y la violencia machista

elkarrekin podemos reitero apoya claramente la pnl planteada por los socialistas vascos y los nacionalistas y estamos

sí muy brevemente para agradecer el apoyo que todos los grupos políticos van a dar a la proposición no de norma presentada es

y el sistema de justicia gratuita el que no esté la consejera presente en este pleno no significa que no dé un respaldo unánime y sin fisuras

acceder a la justicia para reivindicar sus derechos o para defender sus intereses desde la viceconsejería se mantienen contactos permanentes

para en función de las posibilidades actuales que existen ir mejorando y dignificando el sistema de turno de oficio y de justicia gratuita eso me congratula que nos lo solicite desde el partido popular y simplemente extender

en aquellas comunidades en las que él tiene esa decisión muchas gracias

eskerrik asko brevemente también para hacer algunas puntualizaciones a lo manifestado respecto a lo que decía la señora
goirizelaia como bien adelantábamos tenemos

un problema hasta ahora inexistente se puedan generar otros problemas con la tramitación de esta proposición de ley con esa solución que aludía el señor ruiz de arbulo y hacía referencia al turno de fallido de cuál hemos debatido de cara a incorporarlo o no incorporarlo en la proposición no de ley en este sentido

de euskadi hay un acuerdo del gobierno vasco con los colegios oficiales

y sí que es cierto que en la proposición de ley que se está tramitando en el congreso

podría dar lugar a interpretaciones que generasen como decíamos un nuevo problema por eso yo creo que como hemos hablado lo que se puede hacer dado la unanimidad en esta cámara es instar a nuestros representantes que todos estamos representados en el congreso de los diputados

esta cuestión y respecto a lo que decía el señor ruiz de arbulo

en una cuestión que es que no ha sido de manera gratuita es decir este intento de modificación del criterio

creo que en mi intervención inicial hablaba de una posible intencionalidad recaudatoria

pues era detraer importantes cantidades económicas un veintiuno por ciento de estas cantidades de las comunidades autónomas que tienen transferida la administración de justicia para ingresarlas en forma de recaudación de iva en la hacienda española

hay un precedente no solo la sentencia del dos mil dieciséis hay un precedente de otra sentencia

y ahí no hubo ninguna consecuencia sí que es cierto que con respecto o tras la sentencia del dos mil dieciséis hay una consulta vinculante pero también es cierto que

hay una cosa curiosa que es que de hecho la hacienda ya estaba actuando en este sentido es decir que anteriormente a la consulta vinculante de enero de dos mil diecisiete

en relación con estos ingresos percibidos por el turno de oficio en ejercicios anteriores si bien el tribunal económico administrativo en este caso de las islas baleares

en el mes de noviembre es decir mes y medio antes de ese cambio

que los abogados de oficio tenían razón por lo tanto yo creo que

sí que hay o puede haber una solución ya la había y sí que lo que conviene es hacer una reflexión en cuanto al procedimiento llevado a cabo es decir quizás el cambio de criterio

y haber mantenido esas conversaciones con los colegios oficiales con el consejo general de la abogacía con las comunidades autónomas y después haber adoptado la decisión y yo creo que aquí se le fue de las manos el tema al señor montoro no midió bien dos variables importantes la primera las reacciones masivas en contra de este nuevo criterio que iba a recibir

que el pp que el partido popular ya no tiene mayoría absoluta en el congreso por lo tanto para terminar quedarnos con lo positivo de este tema es que se van acabar con varios meses de incertidumbre y protestas que la nueva regulación que va a consagrar el criterio asentado desde mil novecientos ochenta y seis por la dirección general de tributos

al menos en este aspecto esperemos que no genere otros problemas

gracias señora presidenta señor zorrilla yo creo que es importante tener en cuenta el transcurso cronológico de los hechos

la decisión de que no tribute es del año mil novecientos ochenta y seis el criterio inicial

la legislación del beneficio de justicia gratuita y la creación de los turnos de oficio es del mil novecientos noventa y seis los términos en los que la ley lo define

retribuciones y compensaciones y a la luz de lo que ahora interpretan los tribunales de la unión europea eso está

de la dirección general de tributos que tiene que dictar las resoluciones yo no sé cómo se piensa usted que funciona el gobierno que los funcionarios actúan al dictado de lo que dicen los superiores políticos dentro del ministerio no lo hacen conforme a derecho y aquí nadie ha puesto en duda de que esa decisión de la

no sea conforme a derecho nadie lo ha puesto en duda porque es que es conforme a derecho el problema es cómo se ha interpretado una ley nuestra que tiene más de veinte años por los tribunales europeos qué hacemos modificamos la ley si es que es muy sencillo dónde está en afán recaudatorio del señor montoro cuando reconoce y dice explícitamente tanto él

semanas después de conocerse esa decisión esa consulta vinculante que ni los profesionales ni los justiciables se van a hacer cargo del iva sino que van a ser las administraciones públicas

lo va a pagar el gobierno vasco se lo va a pagar a las diputaciones que son las que recaudan si es hacer circular el dinero no hay afán recaudatorio yo entiendo que usted tiene que hacer el discurso si a usted la solución le ha parecido fantástica y maravillosa se cambia la ley porque la

es decir si venimos aquí a hacer el discurso del pim pam pum contra el señor montoro pues lo mejor es mirarse las cosas mirar las cronología de los hechos leerse las resoluciones

simplemente decir que está conforme que apoya el beneficio de la justicia gratuita que es lo que hacemos todos

ruiz de arbulo jauna elkarrekin podemos bai uria jauna zurea da hitza en mi opinión
nunca se tenía que haber aplicado de forma automática a este proceso de encarecimiento de la asistencia del derecho

ni a la administración autonómica ni a los colegios de abogados para su gestión

tiene que ver con una conciencia política no es un problema funcionarial no es un problema técnico no es un problema de aplicación de lo que dice de los tribunales europeos es un problema de análisis y de plantear como el derecho a la salud como el derecho a la educación como otros derechos que son asuntos que pueden ser

objetos de recaudación y objeto de ahorro pues más de ocho mil

en la pasada legislatura en salud y educación solamente quiero decir que si no vemos esto en el contexto y en la cultura

no se entiende nada no es un tema mecánico no es un tema técnico es un quebranto de derechos la posición de elkarrekin podemos es clara nada más que apoyar

esta proposición no de ley que debe retomar la iniciativa por parte de este parlamento y por parte del gobierno para mejorar las condiciones de los abogados y abogadas en los turnos de oficio y garantizar el acceso a la justicia de la gente

de la rgi con pasaportes falsificados el yihadista de vitoria que cobraba mil ochocientos euros los miembros de la trama que estafa a lanbide que sacaron dinero

el control de estas ayudas es un coladero el imán investigado por abusos cobra mil cincuenta euros de la rgi y otros quinientos por su cargo

podríamos seguir pero todas hemos leído esos titulares o hemos oído tertulias o todas hemos tenido oportunidad de leer artículos

de muchos millónes de euros cobrados indebidamente aunque hayan sido en muchas ocasiones pagados indebidamente y no cobrados indebidamente de la incorrecta utilización de la prestación

de subsidios sociales artículos que han generado un debate falso que parte de transmitir a la ciudadanía la existencia de un supuesto fraude generalizado que a más

un debate que hace pensar que el problema de la rgi son las personas que lo reciben y no el sistema

otorga nosotros podemos entender que las noticias anecdóticas en torno a la rgi molestan a la ciudadanía sobre todo si no se plantean de manera correcta pero nos corresponde también a nosotras ponerlas en el lugar que tienen y subrayar y defender

de sus perceptores porque no podemos dar ni un paso atrás en los derechos sociales estrategia horiei eraginkortasunez eta era positiboan aurre egitea funtsezkoa dela iruditzen zaigu

pero parece que con un punto distinto al que hemos tenido hasta ahora

a que no vayamos a tener el consenso necesario para sacar adelante esta iniciativa yo no voy a repetir los titulares que ya ha mencionado muy bien la señora kortajarena no creo que haga falta pero sí quiero trasladar eh bildu pone hoy sobre la mesa la propuesta para realizar una campaña potente duradera y dotada

la herramienta de la renta de garantía de ingresos para dar a conocer el derecho subjetivo y reforzar como no puede ser de otra manera la cohesión

accesible a toda la población nosotras apoyamos esta propuesta porque entendemos que no podía ser de otro modo esta propuesta se acompaña también

para eliminar comportamientos racistas o xenófobos que

hasta ahora para hacerlo con ellos con ellas implicando herramientas que ya existen en el propio gobierno como la red era berean porque entendemos que es una herramienta que se puede y se debe aprovechar la rgi es un derecho subjetivo

sabemos que los millónes que cuesta mantener este sistema sabemos también que hay que velar por su viabilidad pero

que esa viabilidad no puede ser a costa de permitir determinados discursos porque es una herramienta fundamental y a la vista los datos

población consideramos también que el hecho de los matices que introduce la propuesta de la señora kortajarena en relación que esta campaña sea duradera y dotada de los medios necesarios para prestigiar

es más urgente hay cada vez más población que aún con un empleo podría acceder a la renta de garantía de ingresos y que hoy no lo hace por desconocimiento por miedo o peor

agredir o robar recordamos por si alguien se le ha olvidado que el perfil medio de persona perceptora es mujer mayor jubilada insistimos en dos mil dieciséis de seiscientos sesenta y tres mil setecientos noventa y siete personas titulares

beneficiarias directas o indirectas ha habido trescientos noventa y dos casos de fraude

inadecuado uso inadecuado que por si no lo saben podría ser por ejemplo que una

cosas que no me estoy inventando que son casos que yo misma he acompañado por si generase

creo que tenemos el deber de buscar mecanismos para mejorar ese uso indebido y creo que campañas como esta y prestigiando la herramienta

a ello nosotras entendemos que no es posible que las únicas noticias que salgan en medios de comunicación o prácticamente las únicas con respecto a este tema sean grandes titulares que hacen referencia

pero que dan morbo y por lo tanto pues venden debemos con nuestra complicidad o nuestro silencio contribuir a esto

con esta enmienda de transacción un libro blanco que como en otras ocasiones se ha publicado desde otras organizaciones para los medios de comunicación sirva de manual

que acompañe esta acción además de repercusiones económicas porque si la motivación que lleva a sacudir o vender el morbo es lo económico lo económico

también lo que contribuya a parar este tipo de titulares conocemos otras herramientas que hay en el gobierno para valorar esta discriminación que emiten meramente

no sexista de la publicidad y la comunicación en dos mil dieciséis tramitó cuarenta y dos quejar en total

diecinueve es decir más de la mitad vemos que

solo emiten recomendaciones no siempre ayudan a cambiar y creemos que los cambios aquí no pueden esperar no porque estemos contra que cada cual publique lo que quiere sino con que cada cual publique lo que quiera con medios públicos pero bueno voy a volver a al rgi que hoy es lo importante

estamos abonando el terreno para que la cohesión social en euskadi se rompa esto me preocupa y me aterra me aterra que se confirme el hecho de que aunque

población a proteger sobre la práctica se estén convirtiendo en un conjunto de personas a las que temer me preocupa y me aterra que sean personas que no parecen merecer ser sujetos de derecho personas que nos den miedo tal vez simplemente porque nos hagan enfrentarnos a que la pobreza también pueda pasarnos a nosotras hoy quienes cobran la rgi son cualquiera de nuestras vecinas y vecinos en este parlamento lo hemos dicho muchas veces y lo sabemos son la señora que limpia portales el camarero del bar de abajo la señora que tras toda una vida de cuidados se ha quedado con una pensión miserable las nuevas vecinas que perdieron el trabajo en primera instancia son personas jóvenes que tuvieron niños o niñas y se quedaron solas se quedaron en desempleo empresas de construcción que se han ido a pique cuando pinchó la burbuja inmobiliaria somos cualquiera de nosotras que estamos tratando de buscar herramientas para protegernos personas que están quedando en los márgenes de la sociedad y a las que encima condenamos a un discurso

personas sujetos de derecho y entendemos que una campaña que esto lo refuerce y se quede fuera de las paredes de esta cámara también es necesario

da pie a permitir que siga creciendo el racismo o el clasismo

da pie a que no seamos capaces de pensar en que

da pie a que la solidaridad no sea importante da pie a que no protejamos un sistema que es fundamental entendemos que si la propuesta de hoy no sale adelante estamos dejando que la aporofobia campee a sus anchas porque propuestas como la red anti rumores hacen que estos elementos

pero no valen solos sobre todo si hay toda una maquina mediática que está incidiendo constantemente en el mensaje contrario debemos hacer más

a tener en cuenta los elementos que contiene de cara al proceso de reforma porque tenemos por delante un periodo

y yo quiero dejar algunas preguntas a esta cámara qué país queremos

o queremos un país en el que merezca la pena vivir porque si tropieza

no te vamos a criminalizar o a considerar una rémora o un parasito por ello

es eso una oportunidad para levantarnos la garantía de ingresos es un derecho y como tal debe ser una red

y orgullo una red que se conforma en un sistema pensado para que nadie se quede atrás un sistema que debemos luchar por mejorar como ya he dicho en más de una ocasión pero también por defender como esta propuesta trae hoy a esta cámara un sistema que debería hacernos temblar de rabia ante quien lo cuestione y no hacernos

ninguna concesión un sistema que desde luego nos hace más fuertes y que tiene muchos márgenes de mejora pero que no puede permitirse

considero que este es el mensaje que tenemos que lanzar uno que nos ayude a condenar a quien realmente nos empobrece con sus fraudes multimillónarios uno que no permita que las voces que suenan en torno a herramientas fundamentales como la rgi sean truenos

en ser criminales o en que les roben la dignidad tenemos el deber de poner en valor esta prestación y de hacerlo con las herramientas que están en nuestra mano con las que ya existen con las que están propuestas pero también con las que se nos ocurran tenemos el deber de mirar hacia delante desde la óptica de la oportunidad desde las ganas de construir

tenemos el deber de construir discurso en positivo uno en el que nadie salga estigmatizado ni criminalizado un discurso que defienda esto como un derecho irrenunciable

ikusi ondoren la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social del año dos mil ocho modificada en el año dos mil once a través de un acuerdo

partido popular configura efectivamente el acceso a las prestaciones económicas previstas en esta ley con un derecho subjetivo

de vivienda lo configuran así no porque hoy aprobemos una iniciativa un acuerdo entre el grupo proponente y uno de los grupos enmendantes

en el que nos proponen que se realice una

elabore un libro de estilo por lo tanto es la ley la que configura estas prestaciones como derecho subjetivo y tenemos que decir que de eso además nos alegramos y además contribuimos

en el año dos mil ocho de forma muy activa además el partido popular intentando mejorar el texto y dando además una solución que lo he dicho a veces

a las pensiones que no llegaban a la cuantía establecida precisamente para que pudiera ser una fórmula válida y no fuera objeto de recurso por parte del gobierno

esa previsión en la ley tal y como hoy la conocemos a raíz de una enmienda del partido popular por lo tanto contribuimos de forma real y eficaz configurar ese derecho subjetivo obviamente

dutenek legeak ezartzen dituzten baldintzak betetzen badira efectivamente consideramos que tenemos un sistema de protección afianzado de los más avanzados no solo comparativamente con el resto de las comunidades en españa sino también en el resto de europa decía la señora guanche que se dedican muchos recursos pues efectivamente se dedican muchos

de las administraciones públicas especialmente el gobierno vasco realiza un esfuerzo importante habilitando seiscientos millónes de euros en el último presupuesto los anteriores la cuantía fue un poco menor pero sí que es cierto que luego con la ejecución presupuestaria y precisamente porque estamos hablando de derechos subjetivos hubo que habilitar más recursos para dar

a las peticiones que se habían cursado pero a la vez pentsatzen dugu sistema hobetu daitekeela consideramos que el sistema se puede mejorar y es manifiestamente mejorable y

déficits que lo hemos detallado y los hemos detallado a lo largo de todas nuestras intervenciones tengo además en este sentido que recordar que las dos primeras intervenciones

que presentó el grupo popular en esta cámara tenían que ver con una reforma modificación de la normativa de la renta de garantía de ingresos

servicio vasco de empleo para ponerlo también definitivamente a favor de la empleabilidad estas afirmaciones no las hace el partido popular de forma gratuita consideramos además que han sido avaladas por los múltiples datos y variados datos que nos ha dado

en relación a este tema también proporcionados a partir de iniciativas del grupo

yo sí que tengo que decir y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y también a propósito de los debates que ya se han sustanciado en esta cámara a raíz de las iniciativas del partido popular que no estaríamos en la situación que estamos si obviamente el ejecutivo de urkullu el gobierno de urkullu del señor urkullu que además ahora está presente en este

pues hubiera hecho los deberes la legislatura pasada nosotros lamentamos que no fuera así y por eso al principio de la legislatura de esta legislatura consideramos absolutamente oportuno volver a retomar

de las reformas o de la reforma que según el compromiso también adquirido por la señora artolazabal que también está aquí presente en un diálogo

dará satisfacción a las expectativas generadas y también a las necesidades

deficiencias del sistema evitar las situaciones abusivas que las hay las irregularidades salvaguardar los derechos de los más débiles corregir las múltiples deficiencias del sistema y conectar definitivamente el sistema

los que perciben ayudas sociales los perceptores de las ayudas sociales a la empleabilidad y evitar la cronificación

de la reforma y esperemos que esa reforma que según el compromiso del gobierno y de la propia

pues lleguen en la fecha prevista y sobre todo que cumplan con los objetivos a los que desde luego del partido popular creemos que tiene que dar

y en ese sentido señora kortajarena señora guanche sí quería recordarles que precisamente

porque es un tema que preocupa claramente a los ciudadanos en este parlamento se presentó una iniciativa legislativa popular suscrita por más de cuarenta mil firmas

muy concretas para configurar un sistema justo y que las ayudas realmente llegaran a las personas que necesitan

se planteaban modificaciones para por ejemplo precisamente que aquel que aparte de la vivienda habitual tenga un trastero por ejemplo pues pudiera comprar la rgi y no quedarse excluido como sucede

o se establecían condiciones a la hora de percibir la rgi que es algo que espero que también recoja

de bastante sentido común ques que alguien que tenga antecedentes penales pues no sea perceptor de la rgi por la comisión

delitos por lo tanto ustedes querrán mirar hacia otro lado

gracias a que también han sido publicadas por los medios de comunicación pues las conocemos y en ese sentido yo

de los medios de comunicación la información que nos dan también a los casos

perceptores que han sido acusados de drogas que tenían antecedentes penales

o que haya otras personas que también yihadistas que recibían mientras combatían en otros países o personas

porque al final estamos hablando de personas obviamente que

fallecido por lo tanto creo que eso no es cuestionar el sistema poner esas realidades encima de la mesa es hacerse eco de lo que pasa y yo creo que precisamente la responsabilidad del gobierno de urkullu lo que tiene que ir es por subsanar todas esas deficiencias eso los huecos que tiene el sistema que posibilitan estas

muchas gracias presidenta señorías hoy vamos a debatir una propuesta presentada por el grupo eh bildu referente

para prestigiar y dar a conocer la prestación y derecho subjetivo de la renta de garantía de ingresos el grupo proponente planteaba en su iniciativa que el parlamento inste al gobierno a que diseñe y presente ante este parlamento en el plazo de dos meses una campaña presente y duradera

con el fin de reforzar la cohesión social y con capacidad para acceder a todos los tramos de edad ámbitos y tipo de población pues bien mi grupo parlamentario no está de acuerdo con realizar esta campaña informativa

pero no en estos momentos y voy a explicar las razones próximamente

del año pasado que el gobierno elaborara un informe de diagnóstico específico de todos los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos y además la enmienda transaccional a la que llegamos el grupo socialista

eh bildu y elkarrekin podemos marcaba un plazo de cinco meses para que el gobierno presentara ante la comisión de empleo y políticas sociales y juventud el resultado de este informe

y ya se ha pedido la comparecencia en el parlamento por parte de

lo recogido dentro de este informe se establezca luego el mecanismo más adecuado para proceder al estudio del mismo en el mes siguiente dando participación en ese proceso tanto a instituciones como a los agentes relacionados ayudas sociales para que sirva así luego para proceder luego a la revisión de la normativa reguladora de la protección social actualmente vigente

de ingresos es decir no parece oportuno cuando estamos a punto de debatir sobre los cambios normativos para mejorar la renta de garantía de ingresos

pongamos en marcha una campaña informativa dando a conocer los requisitos existentes en la actualidad y la situación actual no es mejor realizar esas modificaciones como está previsto

ese proceso y luego proceder a llevar a cabo esa campaña potente que dé a conocer esos nuevos requisitos conforme a la nueva normativa que se nosotros creemos que sí que eso es más lógico y es más eficaz y estamos de acuerdo como he dicho en realizar esa campaña pero no en estos momentos en el momento adecuado cuando se haya terminado el proceso que acabamos de iniciar y esa situación no tiene nada que ver

sociales que sí aprobamos por unanimidad en este pleno

una reciente legislación aprobada con un derecho subjetivo adquirido por los ciudadanos desde el veintiséis de diciembre y todos los grupos parlamentarios

en que evidentemente este era un momento adecuado para poner en marcha esa campaña informativa y así lo aprobamos en el pleno del nueve de marzo pero como he dicho la situación es diferente la normativa ya estaba aprobada ya estaba reconocido el derecho subjetivo y era el momento de ponerlo

los socialistas vascos hemos manifestado siempre ante esta cámara que estamos a favor de mejorar nuestro sistema de protección social y lo seguimos manteniendo hoy aquí en este pleno es importante recordar que tenemos

en euskadi bueno pero que hemos considerado que se puede mejorar y en eso estamos

la crisis y situaciones que pueden quedar excluidas conforme al momento y la situación actual que

estudiar y que hay que llevar a cabo y poner en marcha esa modificación de la renta de garantía de ingresos con el fin de que la misma llegue al mayor número de ciudadanos posibles y que además se ha de conseguir incrementar esa social porque el objetivo de nuestra protección social tiene que ser que cada vez haya menos personas que necesiten ayudas sociales porque se han podido incorporar al mercado laboral y tener empleo pero creemos que es el momento de modificar esta norma como he dicho para y luego llevar a cabo esa campaña informativa además se acaban de publicar recientemente los nuevos criterios de aplicación de la renta de garantía de ingresos con el fin de que sean conocidos por todos en la web de lanbide de tal forma que

cuáles son esos requisitos a la hora de resolver conforme evidentemente a los requisitos existentes en este momento en la normativa vigente con carácter previo a proceder a la modificación a la que he hecho referencia en segundo lugar el grupo proponente señalaba que quería protocolizar

los comportamientos racistas y xenófobos que pueden ser fomentados desde los medios de comunicación

y en caso que se considere que no lo han aplicado se castigue a estos medios de comunicación económicamente quitándoles las subvenciones y las ayudas

o las inversiones en publicidad que se pueden llevar a cabo en esos medios de comunicación desde luego mi grupo parlamentario siempre ha manifestado aquí que evidentemente

con que se orienten las informaciones en esa materia en una línea racista y xenófoba como se ha hecho en los últimos dos años fundamentalmente pero de ahí

cerrándoles un libro de comportamiento que puede estar bien pero no

se quiere un libro para orientar en el comportamiento es que si no lo cumplen ya estás pidiendo

por no seguir esos criterios que se marquen en ese libro entonces ahí ya estamos rozando el que estamos cortando evidentemente la libertad de expresión de los medios de comunicación aunque no nos guste

mi grupo parlamentario tanto en la anterior legislatura como en esta que no estamos de acuerdo en que se orienten precisamente esas informaciones en una línea racista

es por ello por lo que no vamos a apoyar la iniciativa original tanto por las razones que he planteado

como las razones que he planteado respecto al segundo y nosotros lo que vamos a defender

a la totalidad que hemos presentado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista y no estoy de acuerdo con la

porque ha vuelto a repetir como ya se ha dicho lo mismo de siempre cuando se habla de este tema siempre

discurso y como es el mismo discurso de siempre pues evidentemente nosotros consideramos que ahí como en otras ocasiones en esta tampoco íbamos a entrar

donde se reconoce que el sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión social ha sido construido gracias a la solidaridad del pueblo vasco y se compromete a crear este parlamento discursos responsables e integradores evitando relatos

discursos integradores e inclusivos evitando y denunciando el uso de un lenguaje racista y xenófobo también insta al gobierno vasco

al máximo la difusión de sus estudios e informes insta

al gobierno vasco a que una vez alcanzado el amplio consenso para consolidar y mejorar el sistema de garantía de ingresos e inclusión social realice esa campaña de comunicación que dé a conocer dichas modificaciones y así se recoge además

puntos en el acuerdo de gobierno que firmamos entre el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista y aquí en esta iniciativa

por todas estas razones es por lo que mi grupo

la enmienda a la totalidad firmada por el grupo nacionalista vasco y grupo socialista vasco
que considero que en estos momentos es la más sensata y la más coherente muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak arregi anderea

gizarte babes sistema indarrean dagoela euskal gizartearen solidaritateari esker es importante tener presente que hemos de ser solidarios hoy y además hemos de ser capaces de continuar siéndolo en el futuro

para nuestros hijos y nietas y las generaciones venideras nos parece imprescindible defender también el futuro del sistema así como sus sostenibilidad como además se ha recogido en algunas de las iniciativas que se han aprobado por unanimidad en esta cámara

y actitudes de algunos representantes políticos dirigidos a poner en el punto de mira la renta de garantía de ingresos creemos que flaco favor hacen a conseguir una sociedad solidaria y cohesionada y flaco favor hacen a la convivencia ekimenak eskatzen duenaren muinera joanda lehen puntuaren inguruan

askotan ematen ari dira nos parece que aun compartiendo su objetivo

pidiendo al gobierno en concreto al departamento de empleo y políticas sociales un libro de estilo es como matar una mosca a cañonazos

no podría obligar en ningún caso al ámbito privado ni en concreto

además se recoge en ese apartado segundo de su enmienda transaccional el tema de la publicidad y subvenciones que se nieguen pero aquí podríamos entrar en contradicciones legales porque existe legislación que expresamente dice que determinados anuncios etcétera han de hacerse en los medios de comunicación de mayor tirada de la provincia o de la comunidad autónoma etcétera por lo tanto

respecto a la autocalificada enmienda parcial de modificación de podemos creemos que se trata de una enmienda de adición que tampoco contará con nuestros votos por lo expuesto hasta ahora y sobre todo

propaganda y ahora en cambio solicitan una campaña potente

nos parece que no es razonable cuando menos en cuanto a la enmienda del partido popular el punto primero

y que son el eje de su discurso político en relación al sistema vasco de protección además creemos que no tiene relación directa con el tema que nos ocupa hoy

el punto segundo es lo que ya está haciendo el gobierno la modificación de la ley se está preparando ese informe que va a servir de base para que nosotros podamos debatirlo aquí en el parlamento y a mediados de mayo ya está solicitada

que servirá de base o y guion para la mejora de la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos por lo tanto lo que solicita estará en el parlamento mucho antes que el plazo de cuatro meses que solicita ez dugu babestuko ezta

iva es muy superior a las cantidades que perciben por rgi

y aes además de la aportación demográfica que realizan que también arroja datos muy positivos creo que es importante poner en valor

parece que solo nos quedamos con las cosas negativas que se publican

nunca las mencionamos creo que es importante incidir también en estos informes que además con datos objetivos ponen en valor la aportación

medio centenar de medios de comunicación y agencias de publicidad de euskadi se comprometen con un código deontológico de comunicación y publicación no sexista

señora sánchez con habérnoslo comunicado

nosotras también vimos que teniendo en cuenta que se traía

esta discusión y que efectivamente la señora artolazabal había ya comunicado su intención de presentar esas reformas o las propuestas

pues nos parecía bastante prudente que después de ese proceso participativo que se tiene que dar para llegar a ese consenso tan esperado pudiéramos esa campaña de comunicación yo creo que sin más las posturas eran diferentes en este punto eran muy diferentes desde un principio y nuevamente hemos visto que

pretende abordar el tema matando moscas con cañonazos pero lo que no tengo muy claro es cuál es la alternativa que plantea este gobierno para hacer frente a esas estrategias que se nos marcan cuál es la alternativa que presenta este gobierno para hacer frente precisamente

a todas estas cuestiones que aparecen en la exposición que hemos hecho anteriormente cómo la señora artolazabal va a liderar un proceso de reforma desde los consensos

constantemente en esa línea entonces esto es matar moscas a cañonazos pero me gustaría saber cuál es la alternativa que nos plantean porque la verdad es que en la enmienda más allá de recoger cosas que son muy interesantes tampoco plantea

las cosas cuestan dinero claro que sí a nosotras nos parece que el dinero invertido en la ciudadanía merece la pena desde el primer hasta el último euro

insinúe que hacer esta campaña tendría un coste que no merece la pena invertir porque desde luego a mí se me ocurre pues yo que sé reciclar la subvención a la fundación popular de estudios vascos

poner en marcha esta campaña un par de cosas más

no una ayuda construir discurso también pasa por eso señora garrido vuelvo con usted qué aporta su discurso y qué aporta saber que una persona que cobra la rgi ha cometido un delito de verdad se lo pregunto

de verdad porque es que no lo entiendo yo creo que el sistema

de velar por las personas que han cometido delitos tiene un camino el sistema de protección social tiene otro camino y mezclar una cosa con la otra es mezclar churras con merinas cuando rodrigo rato o

creo que nadie cuestiona que tengan derecho a la salud a pesar de ser delincuentes

que hay que pensar un poco bien lo que estamos diciendo porque estamos jaleando a una parte de la población contra otra y eso no solo no es justo sino que es una irresponsabilidad

planteado y tal vez intentado llegar a un acuerdo en todo caso señora sánchez usted ha mencionado que no es oportuno el momento

el momento oportuno en el que va a haber un montón de titulares y en el que debemos más que nunca cuidar el discurso que hacemos en torno a este tema insisto nosotras no estamos en contra de la libertad de expresión sino en contra de financiar determinados discursos con medios públicos

ya he dicho que el dinero invertido en la ciudadanía bien invertido está si no estaba de acuerdo con el libro de estilo a mí sí me gustaría de verdad si no ahora en algún momento que nos sentásemos a pensar qué es lo que proponen porque yo al igual que ha mencionado la señora kortajarena me quedo con dudas

en primera instancia poner en valor porque me parece que son muy buenos estudios y que son muy buen equipo de trabajo pero sí que también lanzamos la pregunta hasta dónde llegan esas publicaciones del ikuspegi en relación

en todo caso sí que insisto en algo que a mí me ha enseñado la propia red antirumores del gobierno vasco

y por otro lado que los rumores no solo se desmontan con datos o casi nunca se desmontan con datos más bien solo una última cosa

me alegro del tono y sobre todo espero y quiero dejar aquí como último momento de mi intervención que seamos capaces de construir

en lo que viene porque creo que tenemos una oportunidad pero desde luego estoy segura de que tenemos una responsabilidad muy grande mila esker besterik gabe eskerrik asko

y también siguiendo con el mismo tono obviamente porque la crítica política desde luego no nos tiene que llevar al insulto y a la descalificación

recurren algunas portavoces y lo lamento de podemos últimamente en esta

los parlamentarios de eh bildu en esta cámara para que aprendan a dirigirse con respeto a otros representantes legítimos de los ciudadanos en esta cámara

la apelación ha sido directa a podemos porque obviamente tenía que hacerla lo que llama torpedos

son realidades que se ponen de manifiesto lo ponen de manifiesto los medios de comunicación y lo corroboran los datos también que nos ha ido dando este gobierno y que usted también da y conoce y que son datos oficiales y algunos partidos lo que hemos hecho es

ha sido recurrente en esta cámara a propuesta del partido popular pero no desde la legislatura pasada desde hace mucho tiempo no tengo más que decir que el partido popular ya cuando se aprobó la ley del dos mil ocho ya propuso que no fue

y posteriormente los sucesivos ejecutivos consideraron no solo crear esa unidad de control sino reforzarla como parece ser que ahora va a hacer el ejecutivo del señor urkullu bueno a la señora guache ya le he dicho

en esta cámara dirigido expresamente y específicamente a los parlamentarios de podemos porque mire lo que no le voy a admitir es que falte a la verdad aquí no vale todo no vale todo no vale todo y mira nadie ha dicho aquí ni esta portavoz

sean delincuentes por lo tanto debería retirar esas palabras

y me imagino que usted no estará a favor de que haya delincuentes que cobran la rgi

el partido popular con sus propuestas lo que trata de evitar es que haya delincuentes con antecedentes penales precisamente por la comisión de determinados delitos que cobren la rgi por lo tanto que creo

y creo que debería de ser un poquito más respetuosa con las opiniones de otros grupos con representación en esta cámara porque en política no todo vale

también se lo tengo que recordar y ustedes en este parlamento tienen una vida

les conocerán el acceso a las prestaciones económicas previstas en la ley para la garantía de ingresos

son un derecho subjetivo porque lo marca precisamente la ley por lo tanto creo que la iniciativa de eh bildu y la enmienda de transacción suscrita

creo que no aporta nada hoy en el debate a esta cámara sinceramente creo que su discurso ha venido revestido de una cierta demagogia que

un sistema de protección social más afianzado

múltiples propuestas hemos defendido señora arregi pues ya siento que otra vez seamos reiterativos pero

lo propusimos en nuestras dos primeras iniciativas y obviamente cuando se sustancia

esas propuestas para que de una vez por todas pues configuremos un sistema justo sostenible

y para que el sistema realmente funcione besterik gabe eskerrik asko

bueno señora guanche usted

que no es una concesión realizar la campaña yo creo que he puesto de manifiesto claramente

en que esa campaña hay que realizarla eso también estaba claro

nacionalista vasco porque en uno de los puntos ya decía en qué momento nosotros considerábamos que era el adecuado y por eso no estamos de acuerdo con hacerlo ahora hemos explicado he explicado claramente

igual que hicimos en el ámbito de la campaña del derecho subjetivo a los servicios sociales creo que se tiene que hacer exactamente en el mismo momento respecto de la renta de garantía de ingresos para que así sea mucho más efectiva y que conozcan esas modificaciones justo en el momento que se produzcan

eso es lo que hemos defendido por lo tanto nos encontraremos en un futuro no hay ningún problema hoy no hemos llegado a un acuerdo hoy no va a salir esta iniciativa

los distintos grupos es con que sí que estamos de acuerdo con realizar esa campaña aunque sea en otro momento y yo creo que eso es lo positivo aunque hoy no se vaya a aprobar hoy aquí probablemente ninguna de las enmiendas a la totalidad

no es que no se vaya a conseguir nada es que no se pueden utilizar lo que figura en el libro no se puede hacer un libro orientativo a los medios de comunicación y decir bueno tienen este libro

si ustedes no me cumplen lo que yo les voy a poner en el libro les voy a sancionar con lo cual no es un libro orientativo es un libro

en cierta forma porque le estás recogiendo que si no cumplen lo que marca ese libro

en su iniciativa hacer una sanción porque se le tienen que retirar todas las subvenciones y además no se puede entrar a hacer publicidad

el dinero que supone esa inversión y ahí también estoy de acuerdo con la señora arregi que también ahí incurriríamos

que se tienen que poner los anuncios de publicidad en los medios de mayor tirada dentro de los territorios históricos

se genera una distorsión con la cual evidentemente no estamos de acuerdo y eso que ya he dicho que eso es independiente de que efectivamente estamos de acuerdo con que

un discurso xenófobo o racista a la hora de llevar a cabo esas informaciones que vienen realizando desde hace tiempo en todo lo que se refiera a la renta de garantía de ingresos porque al final lo que hacen es distorsionar la realidad

porque en cierta forma yo creo que ahí en esa forma de plantearlo hay también

que no se puede plantear de esa forma de libertad de expresión de los medios de comunicación claro

porque lo hemos planteado la gran mayoría de los grupos parlamentarios de la cámara con que estén dando esa

aunque otra vez haya vuelto a plantear lo mismo dentro de esta iniciativa y cada vez que se presenta algo respecto a la renta de garantía de ingresos no pierdo la esperanza y espero algún día encontrarla en el consenso con todos los

a la hora de poder llevar a cabo un acuerdo unánime en todo lo referente a mejorar y llevar a cabo todas las

hemen etxerako lanak norberaren buruarekin hasten dira gure ustez eta esaten dugu el parlamento vasco se compromete a crear discursos responsables e integradores evitando relatos que siembren el odio el racismo o la xenofobia guk uste gugandik hasi behar dugula

evitando y denunciando el uso de un lenguaje racista y xenófobo

moduan ezta respecto a podemos respecto a la señora guanche

que si no se aprueba la enmienda transaccional que no se apruebe da pie a que la solidaridad no sea importante que si no se aprueba

a que el racismo incremente creo que esas declaraciones esas manifestaciones que ha hecho aquí que creo que he cogido al pie de la letra me parece que sí no no

precisamente consiguen lo que usted con su transaccional pretendía evitar creo que

cuidadosos en el uso del lenguaje decía

que los rumores casi nunca se acaban con datos podemos compartir pero por eso décimos que lo mismo que los titulares

que compartimos que son devastadores para el propio sistema y para la pervivencia de la pues creo que también es bueno incidir en los positivos y por eso también queríamos recogerlo en la enmienda transaccional y por eso lo hemos mencionado aquí

respecto a la campaña claro que estamos de acuerdo lo decíamos en nuestra enmienda

original hablaba de hacer una campaña en este momento y nosotros no hemos tenido conocimiento de la transaccional hasta que la han repartido poco antes de bajar

podíamos suponer que iba a haber una transaccional pero no que se hubiera modificado el hecho del tiempo y que la campaña fuera después de

adivinarlo de todas formas

una oportunidad y como usted decía señora guanche una responsabilidad muy grande en la modificación cuando se nos presente ese informe que va a servirnos de guión o de base para la modificación mejora efectividad del propio sistema

con el partido popular y creo que el consenso y el respeto al derecho subjetivo y al propio sistema creo que no se pone en duda

el apoyo es unánime y creo que la señora garrido y el partido popular serán capaces también de unirse al acuerdo al que usted hacía mención

y creo para finalizar que esos titulares racistas y xenófobos desde luego como decía en mi primera intervención

desterrados y entre todos tenemos que intentar realizar unos discursos a favor

y dejando a un lado estereotipos y discursos que puedan llegar al odio al racismo o a la xenofobia creo que es labor de todos y de todas empezando por nosotros

al tiempo que lamentan que las medidas propuestas sobre la directiva de retorno son un nuevo paso en la construcción de la llamada europa fortaleza y muestran cito textual

contenían medidas para una política de la unión europea eficaz y creíble en materia de retorno

esta pregunta a la cámara eficaces para qué eficaces para quién

por un lado las medidas plantean recomendaciones concretas a los estados miembros la primera que mejoren la coordinación entre todas las autoridades y servicios implicados en el proceso de retorno cosa que desde luego nos parecería bien si esa protección pasase por garantizar que las personas quieren y tienen a dónde retornar

con la intención nada velada de frenar el número de residentes en situación irregular

cuando se sospeche que la presentación de solicitudes persigue únicamente retrasar la ejecución de una decisión de retorno cómo no

si hay una persona que trata de retrasar el retorno no deberíamos tal vez preguntarnos

necesita retrasar ese retorno siguiente medida que prevengan las fugas mediante la retención de las personas que hayan recibido una decisión de retorno y muestren

y equiparándola con la delincuencia que creen programas de ayuda al retorno voluntario que sean operativos para el uno de junio de dos mil diecisiete y garanticen

la información sobre el retorno voluntario sabían ustedes que si

será esta la información que se dé a la ciudadanía o eso cambiaría también planteaba un nuevo plan de acción en materia de retorno

el aumento de la ayuda financiera a los estados miembros con doscientos millónes de euros en dos mil diecisiete es decir parece que no hay dinero ni posibilidades de cumplir los compromisos acordados

para expulsar a quienes han venido buscando una vida a un lugar

no las haya la mejora del intercambio de información para ejecutar las repatriaciones en propuestas en relación al sistema de información

es decir un espacio que nació para facilitar la libre circulación de personas hoy se convierte

el intercambio de mejores prácticas para garantizar la consistencia y la uniformidad de las ayudas a la reintegración en todos los estados miembros para evitar que los países de origen favorezcan los retornos desde países que ofrezcan ayudas a la reintegración más altas porque parece

en algún lugar el ofrecimiento también a los estados miembros del pleno apoyo de la agencia europea de guardia de costa de fronteras

la formación en las autoridades de terceros países prisa

y asesina una agencia que pide y consume dinero para políticas de control y que pone las fronteras de la unión europea cada vez más lejos

también que no se nos olvide más dinero para vuelos de la vergüenza

ojo nigeria túnez y jordania y en el diálogo también con marruecos y argelia apostando por acuerdos

por lo hablar de jordania desbordada de acoger siendo tan pequeña o marruecos que vulnera todos los días

además de haber condenado y continuar haciéndolo al pueblo saharaui lo dicho una vez más la cara

en el marco de la asociación empleo de un efecto palanca colectivo de manera coordinada y eficaz a través de planteamientos adaptados en relación con terceros países para gestionar conjuntamente

definitivamente este acuerdo está centrado como hemos podido ver en blindar aún más esta tierra no vemos ni una medida que tenga que ver con la solidaridad

de otro color o hablando otro idioma son como nosotras pero nacieron en el lugar equivocado por lo tanto parece que nos sentimos autorizadas a robarles el futuro pero es que además este acuerdo vulneraría a nuestro entender los artículos uno y del tratado de la unión europea que hablan de respeto a los derechos humanos de todas las políticas de la unión cosa

vuelvo a lanzar una pregunta para la reflexión esto es lo que precisa europa esto es hacer caso a las personas a las que representamos que han salido a la calle

cito textual migración en la ruta del mediterráneo central gestionar flujo salvar vidas vemos como contiene una frase este acuerdo que dice lo siguiente la presente comunicación conjunta fija un nuevo conjunto de acciones operativas globales que deben aportar rápidamente todas las partes interesadas

y refugiados en países de tránsito en el norte de áfrica fomentar el retorno a los países de origen y como fin último repito como fin último contener la afluencia de migrantes es una constatación clara

fundamentales consideramos que es fundamental definir el rol que euskadi quiere tener

porque medidas como estas que plantea la comunidad europea solo van a provocar que las cifras aumenten recordamos una de cada treinta y cuatro personas que intentan llegar a europa mueren repito mueren ahogadas en el mediterráneo además estas medidas que plantean aumentan otras cuestiones

hasta los dieciocho meses los periodos máximos de detención persiguiendo de nuevo y ofreciendo cárcel a quien solo lucha

hoy planteamos una enmienda de transacción que nos interpela y que nos ajusta en lo que desde aquí desde euskadi podemos hacer plantea una clara posición de este parlamento y de la comunidad ajustado creo yo a lo que su gente

en primera instancia eskerrik asko a los grupos por la generosidad de haber conseguido llegar a este acuerdo y planteamos

a garantizar que todas las personas puedan acceder a los recursos compartimos como institución la declaración institucional del día tres de abril

para dar la mejor respuesta posible a las personas migrantes y refugiadas residentes en euskadi

garantistas apostando por el cumplimiento estricto de los derechos humanos

significa también negociar sobre la posibilidad de que la voluntad de euskadi en materia de acogida de personas refugiadas se convierta en realidad creo que este acuerdo es un estupendo

para ello quiero agradecer de nuevo especialmente a la señora romero y al resto de compañeras la generosidad por haber conseguido llegar a este acuerdo dejándonos como no todas pelos en la gatera pero poniendo por delante que quien gana

solo en un rincón ensimismado raúl observa el horizonte buscando respuestas indicios de consuelo sobre su situación

él es casi inexistente y ya no es nadie solo es soledad y miseria solo es dolor él era despreciado por la mirada diferente de los otros pero en lo más profundo de sus entrañas hay convicción

hay una luz por pequeña que sea que está ahí su respuesta a la solución

bosa bosa contra viento y marea raúl piensa en luchar aunque sea peligroso por el diminuto rayo de redención que le quede y aunque la probabilidad sea casi nula sí

una y otra vez bosará incluso si tiene que cruzar todo su país andando porque le devolvieron otra vez bosará todavía si tiene que sobrevivir mendigando bosará aunque tenga que sufrir de la manera cotidiana a la que azora aunque tenga que lanzarse al mar en cayucos de plástico hinchados esperando un salvamento incierto bosará porque bosa cuando nos gana el riesgo ya no importa y nos obsesiona

en todas nuestras acciones está siempre presente bosa prefiero bosa a morir

parece que es un fin vamos a creer que los cuerpos sin vida que yacen en el suelo o los cuerpos que flotan en la costa manifiestan su alegría a través de una sonrisa

expresa más bien el alivio de haber dejado este mundo de miseria de codicia de hipocresía de intolerancia de indiferencia o la alegría de haberlo intentado

vuelve a la realidad y piensa prefiero y debo soñar con bosa por muchas vallas por muchos muros

seguirá dando alas a las personas a las que tenemos el deber de acoger eskerrik asko eskerrik asko guanche

eta horren aurrean zer egiten dugu es una autentica vergüenza que existan las fronteras no lo digo yo lo dice arcadio olivares

donde se demostró que tenemos una sociedad dispuesta a acoger y a acompañar

uno de los ponentes del taller de anticapitalismo y un referente en la crítica de las empresas transnacionales

juan hernández zubizarreta explicó el funcionamiento de la arquitectura de la impunidad muy claro que estamos inmersas en una crisis civilizatoria silenciosa provocada por un capitalismo estructuralmente violento cuando nos referimos a él también tenemos que hablar de explotación y en concreto de la utilización del cuerpo de las mujeres como moneda de cambio nos habló de la necropolítica

y enmarcó los asesinatos de líderes y lideresas en esa alianza entre la economía legal y la economía criminal

no se desplaza porque hay guerras hay guerras para desplazar a la gente

siento la necesidad de seguir haciendo incidencia en que esto no es una crisis de refugiados es una crisis del propio modelo las migraciones forzadas

a cabo diferentes gobiernos de intervenciones militares de espolio de recursos naturales venta de armas

en el envió de armas a arabia saudí no hay competencias propias en política migratoria lo sabemos pero sí la hay para velar por la defensa de los derechos humanos mediante el monitoreo de las prácticas que se realizan desde multinacionales vascas en el extranjero qué tipo de mercancías se transportan por nuestra tierras

gracias señora presidenta consejeros consejera buenos días señorías a todos

generosidad y disposición ha sido de todos los grupos parlamentarios

con nosotros yo no me voy a reiterar en mi intervención en el pasado veintidós de diciembre en la propuesta que aprobamos

escuchado en este parlamento con ocasión de este mismo debate en otras comisiones

crisis humanitaria que yo suelo definir más como una grave crisis de solidaridad hay responsabilidades mayores y menores pero la crisis existe y está aún lejos de ser abordada como han comentado es verdad que yo pregunté qué había ocurrido desde hace dos años pero también es verdad que no podemos caer ni en la autocomplacencia y en el olvido me acuerdo que la representante de acnur me decía

en ese sentido sí es verdad que no voy a reiterarme en todos los posicionamientos que hice en nombre del grupo

está claro que nosotros compartimos como la mayoría de esta cámara que la postura de euskadi tiene que ser el respeto del derecho internacional humanitario

políticas que estén de acuerdo con los convenios que garanticen los derechos humanos y de ahí vienen el resto de posicionamientos que hemos mantenido y que hacemos también con respecto a todas las políticas de asilo extranjería

y protección de las personas que lo necesitan y eso lo digo en cualquier medida que se proponga y en cualquier nivel institucional y por lo tanto

que la reiteremos y que efectivamente como decía la proponente no nos conformemos ni avalemos políticas migratorias y de asilo que se empeñen en poner obstáculos y excusas que se traduzcan

inmigrantes en su desesperado intento de llegar a europa por ende con motivo compartimos que las políticas migratorias de asilo de refugio no deben convertirse en medidas represivas ni formularse sin tener en cuenta

ese derecho internacional humanitario y esos convenios internacionales de respeto a los derechos humanos no compartimos las políticas migratorias

control externalización y militarización lo hemos dicho en multitud de

y el objetivo muy distinto sino que será única y exclusivamente el de asistir a esas personas el de gestionarles vías seguras de violencia y del maltrato de muerte de tráfico de personas de acogerlos en países

derechos humanos de fomentar la cooperación internacional sí que es la mejor manera de actuar

para hacerles huir de la pobreza y de la miseria y esa es nuestra responsabilidad es por esas razones que volvemos a resaltar en el punto

y que no tienen los objetivos que yo creo que la mayoría de los y las ciudadanas vascas compartimos pero por eso también creemos que

a nosotros nos toca desarrollar aquello que nos compete por eso los firmantes las firmantes de la propuesta transaccional centramos donde vamos a trabajar en el intergrupo en colaboración con la

queremos dar una respuesta integral a esas personas pero lo queremos hacer sobre un diagnóstico previo de su situación

porque en la asunción como conocen las intervinientes y el interviniente que luego

no es la misma para todos los colectivos este es un colectivo plural no todos tienen las mismas necesidades no todos están en el mismo momento ni vital ni procesal muchas veces con respecto a su situación legal soluciones mágicas para todos sin un diagnóstico efectivo que permita dar la mejor de las respuestas desde las competencias vascas para integrar a esa ciudadanía a esa nueva ciudadanía que nos espera porque además yo creo que el gobierno vasco tiene un compromiso definitivo con esos retos emergentes de integración de esa nueva ciudadanía que todos y todas y compartimos y solo tenemos que desarrollar por tanto

no me repito porque saben que lo haremos y comenzaremos el día veintitrés a trabajar esas soluciones desde un punto de vista

y organizaciones sociales como a otros niveles institucionales que están obligados a intervenir

en esta materia pero también estoy de acuerdo con que

lo que más se puede alargar en el tiempo no puede evitar soluciones urgentes que están en nuestra mano en ese sentido tenemos las propuestas que se han desarrollado por parte de la secretaría de derechos humanos que además están avaladas por la declaración de las defensorías autonómicas

en partir de un consenso un diálogo el trabajo en la mesa de negociación para intervenir en salvar a personas a través de experiencias piloto de corredores humanitarios que permitan salvar la vida de esta persona y sobre todo

en todo este totum revolutum de falta de solidaridad y de organización para prestar la solidaridad que sí existe porque el defecto que tenemos en este momento es que algunas lo he dicho antes

pero las que tienen responsabilidad y quieren actuar ven que tienen que consensuar y dialogar para poder posibilitar esas actuaciones por lo tanto

en lo nuestro y en el nosotros en ellos como nos centramos en ellos y en ellas

que necesitan nuestra ayuda migrantes y refugiados que están poniendo en peligro y su futuro desarrollo vital es por lo que hemos también avalado el último punto de la enmienda transaccional nos parece imprescindible que a la hora de salvar aunque sea la vida de una persona que hoy es una mujer

mucho más mayor un anciano pero mañana puede ser nuestro hijo o nuestra nieta

de una sola de esas personas o la posibilidad de integrarla creemos que poner el más mínimo obstáculo a ese diálogo y acuerdo nos parece una irresponsabilidad yo creo que eso es compartido y como

agradezco de antemano a todos y a todas que con independencia

llegado a este principio de acuerdo sobre el que creo sinceramente que podemos trabajar para seguir manteniendo

de ejemplaridad que lo han hecho desde el inicio de esta crisis gracias eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

eta bai bizitzan y décimos esto porque no se ha tratado este asunto ante ninguno de los órganos legislativos que tienen el control de los ejecutivos

etxea teilatutik hasi no se puede empezar la casa por el tejado podemos presentar una pnl instando al gobierno del estado y a la comisión europea sin realizar

la función de controlar pero como en el fondo

a favor de mejorar la situación de las personas refugiadas y migrantes y en trabajar por las mismas hemos conseguido

el representante del partido popular en este caso especialmente sensible y en el que insisto en el fondo estamos todos los grupos de acuerdo queremos poner

y la voluntad para el acuerdo que todos los grupos hemos demostrado porque compartimos la preocupación por la situación de miles de personas que han tenido que abandonar sus países

en busca de una vida mejor y porque también estamos de acuerdo en la necesidad de ser más proactivos de volver a los valores fundacionales de la propia unión europea creemos

ser mucho más solidaria que debe de hacer un esfuerzo para acoger a todas estas personas y darles una acogida digna y acorde a sus necesidades como

onartuko dugun erdibidekoan estas dos iniciativas son

de la solidaridad del pueblo vasco y de la preocupación y ocupación de las instituciones de este país tanto del propio parlamento vasco como del propio lehendakari a favor de las personas refugiadas y migrantes ayer mismo

la disposición de euskadi a ofrecer un refuerzo complementario a los programas de los estados en acogida a refugiados es un ofrecimiento que se ha hecho un vez más pero bueno

se adquiere en la enmienda transaccional el compromiso de esta cámara para trabajar

migrantes y refugiadas en colaboración estrecha con la secretaría general de derechos humanos convivencia y cooperación adostutako erdibidekotik gauza bi

ikus dezakezuenez sinceramente pensamos que la mejor manera de avanzar como ya lo reitero es manteniendo una postura firme y unánime si es posible pero si no lo más amplia posible

colaborando todas las instituciones y también con los agentes sociales cada uno

que consigan ir dando la vuelta a la trágica situación que están viviendo miles de personas y evidentemente en esta tarea nadie sobra denok beharrezkoak gara elkarlanean

buenos días gracias presidenta consejeras consejero buenos días señorías

se repite vuelve a venir la cuestión en relación con la situación de las personas refugiadas nosotros nos tenemos que reiterar en lo que ya manifestamos hace unos meses

que hay que hacer es trasladar nuestra solidaridad a tantas víctimas de la guerra tantas víctimas del terrorismo

lo que tenemos que tener como empeño y como esfuerzo y cómo la unión europea también trata de hacerlo

o potencia pero en cualquier caso yo creo que buscando acuerdos y también manifestar a renglón seguido nuestra preocupación por

ultras de algunos colectivos de algunos partidos de algunos países

para la políticas de marginación y exclusión esa no es la actitud de la unión europea la actitud de la unión europea es muy tras la búsqueda el acuerdo el concierto de veintiocho de veintisiete

o ineficacias que es verdad pero en cualquier caso seguir por ahí que es la posición que nosotros desde luego vamos a defender siempre nosotros hubiesemos

las mantuvimos hace unos meses y que iniciamos un camino de una andadura con el intergrupo

que representantes del gobierno vasco y del gobierno de españa están teniendo esta misma mañana sobre la cuestión la situación de las personas refugiadas y cómo seguir avanzando en la cuestión hubiesemos preferido esperar pues para ver para hablar yo creo

incidiendo seguimos hablando sobre ese tema pero yo creo que una vez constituido el intergrupo una vez

una vez habiendo participado en el acto recientemente del tres

en relación con las personas refugiadas estábamos cimentando

hay que seguir hablando y hay que seguir debatiendo hay que seguir buscando puntos

quizá algunos de conflicto o de crítica nosotros también entendemos que el marco del intergrupo puede ser y debe un buen ámbito de trabajo sin tener que estar todo el rato

el pronunciamiento y sobre todo yo creo que a veces buscando que se discrepe y que se busque el desencuentro

ya nos hemos pronunciado recientemente pues ahora vamos a trabajar en el ámbito que nos hemos dado internamente y en colaboración con las administraciones en esta cuestión y a renglón seguido pues nosotros también queremos decir que vamos a trabajar

vamos a ver qué frutos dan las conversaciones y los acuerdos que es la clave fundamental y bueno en ese sentido

nosotros compartimos y nosotros apoyamos desde luego decididamente críticamente también en algunas cuestiones pero decididamente en esencia

en contra de lo que hacen otros grupos los esfuerzos que hace la unión europea nosotros somos partidarios señora guanche somos decididamente partidarios de que veintiocho o veintisiete países

tengan políticas en común es difícil ahí sí que se dejan pelos en la gatera también efectivamente y se podrían hacer las cosas mejor pero para nosotros esa es la clave

objeto y materia de discusión pero esa es la clave la agencia europea en materia de migración pues ahí está nosotros sí confiamos en ella

sus pronunciamientos podrían satisfacer de una manera más intensa algunas pretensiones pero efectivamente tiene que haber un instrumento tiene que haber un ámbito de trabajo y ese es

ha habido llamamiento recientemente de la comisión europea pidiendo esfuerzos en la aplicación de las medidas de solidaridad previstas en la agenda o sea que la solidaridad también está ahí bien el grado de eficiencia o de eficacia podrá ser

y valorado pero la conciencia y el postulado están en la solidaridad

se han criticado se han hablado de unas medidas para una política de la unión europea eficaz y creíble en materia de retorno pues

la unión europea y lo tienen que hacer los estados pues ahí están las recomendaciones de la comisión como la de siete de marzo del dos mil diecisiete para lograr esa eficacia se discute también los términos

pero ahí está y el trabajo debe de ser desde luego visto

faltan muchas posibilidades de actuación en esa materia pero hay que seguir desde nuestro punto de vista en esa línea nosotros ya décimos ese planteamiento de respeto a esas decisiones europeas en la tramitación

la proposición no de ley de diciembre pasado pero no sé a veces hay de todas maneras algunos excesos todos los podemos cometer pero

calificar a una agencia europea fruto del acuerdo de los estados democráticos una agencia militarista y asesina

eso no está bien el otro día protestaba alguno por algún planteamiento político en esta cámara se sentía insultada y aludido no sé qué tendría que hacer la unión europea ir a la mesa del parlamento vasco pedir un amparo

se puede criticar pero hay que tener más elegancia o más

o sea no se puede hacer estas críticas es que dan ganas con estas críticas de

con quien hace esa descalificación de raíz de lo que es

es que no es militarilizada es que no dispone ni de equipos ni de guardias de frontera propios no

coordina la verdad es que me hace enfadado cuando he oído esa expresión pero bueno

con mi argumentación descalificar así los postulados las actuaciones de la unión europea y que veintisiete países se ponen de acuerdo

comparto la actuación y tiene que haber agencias y tiene que hacer coordinaciones como la que

es una cuestión muy complicada y delicada pero en relación con ese tema yo desde luego protesto por la descalificación y por el exceso

nosotros vamos a votar a favor del acuerdo que han llegado ustedes

nosotros sí discrepamos en algunas cuestiones la cuestión que tiene que ver con

andaduras o procedimientos pues tampoco es que estemos perfectamente de acuerdo o podemos

reflexión del lehendakari su declaración pues nosotros también podríamos haber lógicamente no tuvimos oportunidad ahí de meter el bolígrafo como lo podemos hacer en las declaraciones institucionales de esta cámara pero bueno en cualquier caso vamos a entender

o sea votaremos a favor vuelvo a decir con las salvedades que ya

en la discusión de la proposición no de ley de diciembre en relación con este tema pero entendiendo el primero pues ratificando esa proposición no de ley pues bueno de acuerdo votamos

del que nos abstuvimos y manifestamos nuestra disconformidad

del acuerdo transaccional comparte la declaración institucional sobre personas

mi grupo yo mismo estuve en ese acto y compartimos reflexiones y

incluir otras cosas vamos a entenderla y a utilizarla como elemento de trabajo desde luego comprometerse a trabaja como un intergrupo pues bueno para eso asumimos y formamos el intergrupo y tenemos que empezar en ese marco quizás

pueden ser un poco canalizados en esa actuación y ya nos habíamos pronunciado

cabe duda que el punto número cuatro en relación con compromiso en la exigencia en los niveles institucionales de política extranjería asilo migración

y bueno ahí han metido el inciso de reiterando su oposición al acuerdo entre la unión europea y turquía esto no lo compartimos pero bueno vamos como está metido ahí en un párrafo pues bueno pues vamos a votar a favor del espíritu del aunque haciendo desde esta tribuna salvedad

inciso y el último pues el parlamento vasco partidario de una actitud proactiva a favor del diálogo y los acuerdo sobre las iniciativas en esta materia efectivamente en este parlamento

generales en la unión europea entre los veintisiete estados que en este momento negocian las políticas nosotros estamos de acuerdo con el diálogo y con los acuerdos en incidir y en progresar en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas
refugiadas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos guanche andrea bertatik

antes para mí es un orgullo que seamos las primeras en posicionarnos y seguir ofreciendo ese compromiso que el pasado tres de abril llevamos

en forma de declaración institucional señor barrio nosotras consideramos que no

que no estamos buscando el desencuentro sino que ante una nueva situación

pasar a esto no obstante lo seguiremos pensando bien de cara a la siguiente porque tal vez es el intergrupo de personas refugiadas el espacio

desde luego blinda los derechos humanos si a usted le ha molestado le ha enfadado que haya dicho que

retiro esa parte la de militarizada no sabe usted que la elegancia no necesariamente tiene porqué ser mi fuerte

humanos y en ese sentido lo quería decir disculpar si no ha quedado claro
y por última instancia agradecer a todas la generosidad y el que hayamos podido llegar a este acuerdo eskerrik asko guanche andrea

desde el escaño únicamente para agradecer la generosidad de todos en el acuerdo hoy estoy un poquito menos desesperada

efectivamente que el acuerdo es importante lo hemos dejado o hemos respondido

que hace falta y la generosidad que se debe hemos pasado

a los hechos de las declaraciones a las acciones y de los discursos a las propuestas sabemos que vamos a hacer un diagnóstico en el intergrupo que vamos a intentar trabajarlo con las personas que conocen la situación las organizaciones y asociaciones y nuestras instituciones

una situación a los distintos gobiernos para que podamos salvar a personas eso es lo que a lo mejor podemos contribuir y solo si contribuimos a salvar a una persona la verdad es que me siento profundamente

la iniciativa que en nombre del grupo popular presento hace referencia al sector turístico concretamente a la ley de turismo que

el veintiocho de julio del dos mil dieciséis justo finalizando la legislatura anterior

afirmaba que para conseguir de manera efectiva los objetivos que se plantean en política turística es imprescindible la coordinación de las administraciones públicas que realicen actividades que tengan relación con el sector turístico y que se llevará a cabo mediante cualquier fórmula prevista en la legislación vigente es verdad que

consenso para incorporarla y es por lo que nuestro grupo estima oportuno

necesario como así se dice en el preámbulo de la propia ley creo que todos coincidimos o podemos coincidir en que la planificación de la política de ordenación

y las líneas de actuación correspondientes deben ser fruto del debate de la coordinación y la confrontación de las administraciones competentes entre los ejes potentes de la política turística deben estar la innovación la cooperación profesional y la coordinación interinstitucional

entre ciudades para no solapar eventos coordinación para

cómo mejorar la competitividad del turismo en euskadi cómo mantener la interlocución y la coordinación constante con todos los agentes y sectores turísticos de nuestra comunidad autónoma coordinación en la ordenación y estructuración de la oferta turística

mensajes y argumentos compartidos coordinar cómo ubicar correctamente los acontecimientos de interés turístico en el calendario de nuestros pueblos y ciudades

entre las administraciones en definitiva señorías lograr los mayores impactos y optimizar los recursos y presupuestos que se destinan

trabajar para cómo hacer crecer el interés euskadi cómo fortalecer la presencia del destino euskadi en las redes sociales para incentivar el intercambio de experiencias entre los usuarios con el objeto de contribuir a mejorar el nivel de conocimiento y prescripción del destino euskadi señorías es muy importante el sector turístico estamos en un momento de pleno auge y hay que buscar todas las oportunidades

autónoma tiene un potencial turístico y para eso es imprescindible la coordinación interinstitucional nosotros presentamos una iniciativa en la que decíamos

hemos llegado a una enmienda de transacción con los grupos que sustentan al gobierno y lo que hemos acordado es que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a constituir con carácter permanente la comisión de coordinación interinstitucional

los ayuntamientos de las tres capitales y un representante de las agencias de desarrollo comarcal de cada territorio histórico para el análisis establecimiento y evaluación de criterios de desarrollo de turismo mice en euskadi creemos que es muy

recogido en la ley porque así se presentaron enmiendas pero que no fue posible y hoy nosotros presentamos esta iniciativa hemos llegado a este acuerdo y no voy a insistir más

muy profundo y ahí se recogen todos los criterios y lo que hacemos es simplemente dar forma a algo que la propia ley se recogía como una intención y que hoy lo que hacemos es formalizar esa intención nada más muchas gracias a los grupos por apoyar y espero que el resto de grupos

breve porque como ha dicho la proponente de la iniciativa

a resaltar en el día de hoy es el acuerdo que hemos logrado y por lo tanto no me queda sino celebrar la transacción

llegado un acuerdo que va a ser beneficioso para los tres territorios vascos que va a ser importante para las capitales

para muchos pueblos y comarcas que están alrededor de esas capitales y que van a tener una oportunidad más al menos de establecer de forma coordinada

el turismo llamado de congresos de negocios de reuniones de eventos

del turismo por el que apuestan muchísimas ciudades en el mundo muchísimas ciudades también en europa porque no solamente es importante para la ciudad

sino que también es importante para el sector turístico de esa ciudad pero también para el desarrollo de servicios como hostelería de las zonas de alrededor e incluso no solamente de las comarcas sino también

en que había una cierta llamémosle así discriminación desequilibrio mejor yo creo que el término mejor utilizado es el de desequilibrio que venía

de donostia san sebastián y eso provocó en algunos territorios al menos en el de gipuzkoa el hecho de que las juntas generales de gipuzkoa allá por junio del dos mil dieciséis

señalando la necesidad de este órgano interinstitucional de coordinación para establecer una serie de criterios de común acuerdo entre los territorios

una equilibrada distribución de los congresos en las comarcas en las ciudades y como digo en los territorios y aquella

por todos los grupos políticos de las juntas generales de gipuzkoa e excepción del partido nacionalista se trajo aquí en forma de enmienda por parte del grupo socialista la pasada legislatura como bien ha dicho la señora lópez de ocariz al hilo del debate sobre la vigente ley de turismo y en aquel momento los socialistas no tuvimos la fortuna

entendiese o comprendiese hasta dónde era importante el establecer un órgano de coordinación interinstitucional

la necesidad de una distribución harmónica de los congresos de las reuniones y de los eventos que se celebran en nuestras ciudades y pueblos y por lo tanto aquello no fue posible pero hoy gracias a la iniciativa de la señora lópez de ocariz gracias al hecho de que también

no tiene ni un año de vida y por lo tanto no parecía lo más oportuno ni lo más sensato

de la actual ley entendimos entre los grupos que presentamos la enmienda que era mucho más factible el utilizar la actual mesa de turismo un órgano asesor también del gobierno para ese desarrollo de la política turística y aprovechar que en lo que es el decreto de creación de la mesa de turismo entre las funciones de este órgano asesor

permanentes para estudiar asuntos que tuviesen que ver o relacionados con el turismo así que

esta enmienda transada encaja bien en este órgano asesor no es la máxima aspiración que los socialistas vascos tuvimos en su momento pero sí que es cierto que bueno da un paso más y creemos además que va a evitar y va

consensuados criterios acordados entre agentes que están muy interesados en el desarrollo del turismo de congresos y de eventos

los ayuntamientos de las tres capitales vascas las diputaciones forales que también tienen competencias en materia de turismo y unos agentes que no aparecían hasta ahora

que era importante y son las agencias de desarrollo comarcal porque el sector turístico tiene futuro el sector turístico es uno de

que tienen su impacto económico importante en euskadi importante también allá donde se celebran todos los congresos y los eventos y por eso entendíamos que era importante encajar y agradezco a la señora lópez de ocariz que tuviese en cuenta

estén presentes en ese órgano de coordinación interinstitucional sin ser instituciones propiamente por lo tanto

para ese desarrollo armónico para ese desarrollo equilibrado del turismo de congresos en euskadi por tanto no me queda si no felicitar a los grupos por el hecho de haberse dejado también los primeros intereses en la gatera hemos intentado que esto sea bueno para el sector porque el turismo de congresos no es solamente importante para los empresarios turísticos con los cuales se concierta

sino que también tiene alrededor suyo sectores importantes como el sector de la hostelería el sector de hoteles de alojamientos e incluso

que ven reforzada su actividad económica gracias al hecho de que se celebren congresos

para lo que son las comarcas y los territorios por lo tanto es importante que euskadi vea de esta manera posibilitado también que forman parte de lo que la agencia que establece como criterios para la promoción del turismo de congresos ahora mismo tan solo hay dos capitales que están en ese ranking del mundo establecido

y es bilbao en el puesto número sesenta y nueve y donosti en el puesto número ochenta y nueve vitoria gasteiz no aparece creemos que este tipo de cuestiones a pesar de que se establezcan esos rankings con unos criterios

de vitoria gasteiz pero entendemos perfectamente que con este órgano de coordinación se podrán solventar muchas de esas barreras y seguramente vitoria y otras ciudades

del mapa de euskadi podrán verse en un futuro en esos rankings y en esos puestos

los congresos y por lo tanto también verán afectados su impulso y desarrollo económico por tanto nada más muchas gracias señora lópez de ocariz por haber admitido la transacción

ha explicado algunas características y correctamente de lo que es el turismo pero por subrayar algo digamos por añadir algo

tractor y dinamizador de enclaves urbanos con vocación turística al reactivar destinos por su carácter desestacionalizador hay que recordar también que el gasto medio de todas la personas que

pues es relativamente alto lo cual evidentemente es interesante para aquella ciudad o comarca que acoge un congreso algunas características diferenciales y definitorias del mice en relación al turismo clásico bueno pues que se trate de un turismo que depende evidentemente de la coyuntura económica venimos de una situación de crisis económica y ahí evidentemente es algo que se ha notado también en la organización

tiene una estacionalidad y tiene una rotación los congresos según la experiencia se celebran más

aunque también hay que subrayar que todas aquellas personas que acuden a un determinado congreso es decir que forman parte del turismo si están satisfechas luego normalmente suelen acudir a ese mismo destino en ese caso ya desarrollando un turismo

según algunos datos que en euskadi el ochenta y siete por ciento de las personas

al mismo destino euskadi en este caso digo bajo la forma de un turismo más de ocio y tradicional tiene un impacto económico evidente tiene un impacto en términos de imagen también para las ciudades y los países o los territorios que acogen este tipo de eventos y

existen toda una serie de factores muy importantes a la hora de que un determinado promotor escoja

a la hora de organizar su congreso hamarkadak dira euskadin lehiakortasun eta garapen ekonomiko eta sozialaren eredu propio bat

aquí que como decía la señora lópez de ocariz efectivamente hace referencia a la ley aprobada en la legislatura pasada y el aspecto central del turismo mice y que nos planteamos con la colaboración

necesaria y obligada es la de elaborar una estrategia integral y común para aunar fuerzas y voluntades al objeto de hacer de euskadi un entorno favorable y propicio de cara al exterior

ese es el objetivo básico que tiene que tener esta comisión interinstitucional se han hecho alusión algunos

de discusión y tratamiento la legislatura pasada

el de ikei en concreto pues un tanto parcial algo reconocido por parte de los propios autores

yo no sé si realmente es la cifra exacta o si en realidad en los años

la inmensa mayoría de esos congresos estaban promovidos por la iniciativa privada por lo tanto simplemente única y exclusivamente entre unos sesenta y setenta y cinco

o congresos organizados por parte del gobierno vasco por tanto bueno esta comisión interinstitucional o este grupo de trabajo en el seno de la mesa de turismo servirá para insisto hacer un análisis de todo eso

hacer de euskadi una oferta atractiva para acoger congresos y ese tipo de eventos que resultan indudablemente muy beneficiosos eskerrik asko

lehendakari jauna egun on guztioi buenos días a todas y muchas gracias señora presidenta el asunto del que nos toca hablar hoy es una propuesta presentada por el partido popular

ahora nos llega en forma de enmienda transada con respecto a la creación de un órgano de coordinación interinstitucional de turismo para que exista una coordinación entre las diferentes administraciones públicas en euskadi desde elkarrekin podemos entendemos que la política turística ha de ser una política transversal y contar con la coordinación y el trabajo interinstitucional la interlocución constante entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para promover sostenible y de calidad entendemos la importancia del turismo como actividad económica y como promotor de riqueza para euskadi suponiendo ya casi el seis por ciento

lo sitúa en el centro del sistema productivo de nuestra comunidad autónoma sin embargo una ley del turismo que como ustedes han comentado

no refleja o deja a un lado de regular una serie de situaciones y de fenómenos que se dan en euskadi dentro del sector turístico no podemos seguir promoviendo un crecimiento cuantitativo basado en las cifras y en los números nosotras apostamos por el desarrollo de un turismo cualitativo y responsable

dependen de los tres niveles administrativos y que esta propuesta de coordinación llega tarde porque hay lugares en euskadi que ya están sufriendo las consecuencias

y descontrolado es el caso de los cascos históricos de donosti y de bilbao donde la búsqueda indiscriminada del aumento de turistas ha supuesto la subida desproporcionada

que compran edificios enteros y los alquilan en exclusiva a turistas a precios desorbitados esto provoca el fenómeno

donde los residentes tradicionales la población mayor y las personas con menos ingresos que no pueden asumir esos precios son desplazadas por inquilinos de mayor capacidad económica y terminan por abandonar los barrios y los centros urbanos además al subir el coste de las lonjas y locales comerciales también el pequeño comercio local es sustituido

cada vez se parecen más entre ellas las mismas grandes superficies comerciales las mismas

y ni un ápice del pequeño comercio autóctono y local que muchas veces es gestionado por los propios habitantes y vecinas del barrio este tipo de fotografías están carentes de la identidad y de la diversidad que fortalecen y dotan de alma a los barrios y municipios

se está imponiendo y la inacción y la falta de coordinación interinstitucional no pueden continuar no podemos seguir favoreciendo y facilitando un modelo turístico que se basa en el primer sector desde nuestro grupo queremos que se promueva un modelo de gestión turística que contribuya eficazmente al mantenimiento y protección del patrimonio cultural y natural en los destinos turísticos vascos que el objetivo sea casi siempre el desarrollo sostenible y se promueva

que se establezcan relaciones con las asociaciones empresariales turísticas con organizaciones no gubernamentales y con productoras y artesanas locales de los diferentes destinos estamos evidentemente a favor de que exista una coordinación interinstitucional que reconozca y fomente la descentralización

sea acabar con el desequilibrio territorial ya que el ochenta por ciento del turismo se concentra en las tres capitales vascas pero esta iniciativa tendría

insuficiente la coordinación con las diputaciones forales y con los ayuntamientos es imprescindible para trabajar la distribución de los flujos turísticos que actualmente se aglutinan en las grandes ciudades no se trata de ampliar la oferta sino

para que repercuta de forma positiva en la economía de cientos de municipios

ocupaciones de vía pública y conflictos vecinales como ya ocurre en algunas de nuestras capitales esta pasada semana santa hemos podido comprobar que la falta de diversificación de la oferta turística vasca ha llevado a la masificación y saturación

que son promocionados hasta la saciedad en euskadi

expertos de la universidad de deusto ante las imágenes de concentración de gente en algunos puntos y la sensación de muchos vecinos y vecinas consultadas

han concluido que hay que ser cautos y tomar medidas para que euskadi no siga el camino de ciudades como barcelona o venecia abogan por descentralizar el turismo y que se promocionen

que no se ejerza la presión sobre un solo punto y que no podemos olvidarnos

ha de reportar beneficios tanto económicos como medioambientales en las diversas comarcas a pesar de todo esto el gobierno

por establecer mecanismos en este sentido así lo dejaba claro hace poco la viceconsejera de turismo isabel muela en sus declaraciones donde aseguraba que

y que la imagen de masificación del turismo en euskadi no es real en esta misma línea han presentado una enmienda a la totalidad donde lo único que proponían

es otra más de las maniobras de este gobierno de postergar y ralentizar el establecimiento de una herramienta eficaz que cuente con la participación de todos los niveles de gobierno finalmente han presentado ustedes una enmienda transada pero que nos parece insuficiente porque solo

y nosotros entendemos el turismo de una forma más global el sector turísticos vasco experimentó el año pasado una mejora también en cuanto al empleo

afiliados a la seguridad social pero este empleo es precario muchas de las personas que trabajan en alguna actividad relacionada con el turismo lo hacen con contratos temporales y en condiciones laborales que rozan la ilegalidad el turismo aporta riqueza a la economía vasca no cabe duda pero generar empleos de calidad

lo que hemos expuesto nosotras vamos a abstenernos ante la enmienda transada porque entendemos que es importante la coordinación interinstitucional

y para diversificar la oferta dando protagonismo a todos los entornos naturales y comunidades culturales pero esta enmienda nos resulta incompleta y llega tarde no solo queremos regular

nosotros entendemos el turismo como algo inclusivo e integrador que no excluya a nadie y acorde a todas las economías y bolsillos en definitiva

se nos presentaran para que en euskadi el turismo sea realmente sostenible social y responsable muchas gracias eskerrik asko garcía andrea

vaya chapuza señora corcuera vaya chapuza señor

vaya chapuza señora lópez de ocariz vaya chapuza que se acaban de marcar a tres bandas con la transaccional que acaban de firmar yo imagino que la mayoría de esta cámara no ha seguido ni de cerca el debate ni conoce los contenidos

que el gobierno vasco a la propuesta de reforma de lanbide responde diciendo que va a arreglar o va a abrir una oficina nueva en barakaldo y ahí se queda la cosa

hay que reforma osakidetza de arriba abajo la respuesta del gobierno es pintar un ambulatorio

ni se toman en serio a ustedes mismos estamos hablando de un sector que representa el siete por ciento de la economía y estamos hablando de una propuesta inicialmente que no tiene absolutamente nada que ver con la transaccional que ustedes por motivos de estrategia y de táctica política

y aparentar una cierta centralidad y ha firmado una transaccional que no tiene absolutamente nada que ver con la propuesta inicial

la propuesta inicial habla tanto en su literalidad como en su justificación de la necesidad de coordinar entre las diferentes administraciones las políticas turísticas y yo voy a parecer ahora que soy siempre el malo que vengo aquí hacer un debate bronco eta benetan esan behar nizuen gaur

porque es un aspecto parcial que es importante lógicamente no le quiero quitar un ápice de importancia

que no tiene nada que ver con la coordinación global de las políticas turísticas además la propuesta que el pnv

parte de un acuerdo previo que existe y que es público con el grupo de eh bildu en el marco del respaldo a la ley de turismo y es corregir los actuales desequilibrios en el reparto de congresos entre los diferentes herrialdes

y reconocido por los dos partidos firmantes entonces solo se comprometen hacer lo que ya estaba comprometido y además de una forma absolutamente parcial que no tiene nada que ver y que no responde claro que les acepte la transaccional el partido popular lo único que significa es que quieren salir en la foto y quieren aprobar una proposición da igual lo que sea entonces es como cuando vas a las rebajas y vas a buscar un jersey pero bueno vuelves con los calcetines da igual

la transaccional que ustedes han firmado empeora los términos del acuerdo que estaba establecido para regular

porque lo que plantean es que dentro de la mesa de turismo se crea una comisión interinstitucional

a los agentes no institucionales de la mesa del turismo de esta mesa va a haber una mesa

y otra mesa global no solo interinstitucional cuántas mesas quieren ustedes hacer para algo tan sencillo como buscar una fórmula equilibrada para repartir sin discriminación

yo creo que debemos tomarnos las cosas con un poco más de seriedad

porque hay miles y miles de empleos detrás y hay como decía anteriormente un siete por ciento del

el turismo tiene un enorme potencial el turismo si responde al modelo que se estableció en la ley de turismo puede traer grandes beneficios pero el turismo de forma incontrolada en este país y en cualquier otro

al entrono natural de desequilibrios territoriales de precariedad laboral

que tienen o competencias o desarrollen actividad en el ámbito del turismo y para eso se tienen que coordinar

teóricamente aceptado de forma unánime y establecido en el ley de turismo el año pasado

beneficios en términos económicos de generación de empleo y también culturales y de otra índole y que al mismo tiempo minimice los perjuicios que puede generar un turismo incontrolado

una de las realidades a las que quería responder y a la que la ley de turismo presenta instrumentos para responder pero esos instrumentos ahora se tienen que llenar de contenido se tienen que desarrollar con políticas concretas entre las diferentes administraciones pero a ustedes

y punto pelota como diría mi compañera entonces

un monumento al despropósito yo entiendo que se pasó de aquel deshielo entre el pp y el pnv a un romance y luego ha terminado en algo todavía más tórrido y que ahora da la impresión de que el pp quiere firmar cualquier cosa incondicionalmente con el partido

pero realmente yo creo que estas frivolidades no son de recibo que podrían haber puesto el listón un poquitín más alto que podrían haber respondido a la temática de hoy que es lo suficientemente seria

de unos grupos que están sustentando a un gobierno una respuesta adecuada y que haga referencia a una problemática que es real yo lo lamento ya digo que al final

pero hay hechos que obligan a ello y cree el ladrón que todos son de su condición verdad pues en esas estamos

y no la tenemos por qué porque alguien de bildu señor casanova tenía muchísima urgencia

y entonces entre otras muchas rechazaron muchas enmiendas que mejoraban sustancialmente la ley y entre las enmiendas había una de creación de un órgano coordinación interinstitucional al que ustedes votaron en contra

de esa enmienda hoy no estaríamos aquí por lo tanto causante de que tengamos una mala ley es usted principalmente es así esa es la realidad

ha mencionado son causa de su prisa y de su supeditación a algunas cuestiones que planteaba

por lo tanto si no hemos conseguido una mejor ley que podía haber sido porque había mimbres porque había enmiendas porque había espacio

y ahora qué le pasa qué le pasa ahora que sigue con el ataque de cuernos sigue tiene un problema

y yo creo que aquí no estamos para cuestiones personales estamos para cuestiones generales en eso estamos para eso trabajamos hemos avanzado lo que no figuraba en la ley

portavoz de podemos también le parece poco pero vamos a ir trabajando en pasos positivos y las cuestiones personales pues para otros momentos

señor casanova no ofende quien quiere sino quien puede

mire chapuza es no presentar ninguna alternativa a una propuesta y luego venir aquí a despotricar contra todo lo que se pone delante eso sí que es chapuza eso es no trabajar adecuadamente

que pueda estar usted molesto porque efectivamente usted pactó con el partido nacionalista vasco la actual ley de turismo usted la pactó luego

que habían sido muchas las prisas que había sido todo muy acelerado un pequeño tirón de orejas a la viceconsejera de turismo que todos tuvimos el honor de ver en aquella comisión

y de aquellos polvos estos lodos porque usted sabe muy bien que los socialistas presentamos en su momento en comisión y luego al pleno mantuvimos la enmienda de la creación del órgano interinstitucional

una coordinación una cohesión territorial en el tema del turismo mice y usted tiene que ser consciente

de coordinación interinstitucional estuviese presente y usted lo impidió usted con su voto lo impidió impidió que estuviese en la ley usted lo impidió porque pacto según dice verbalmente claro es que uno pacta verbalmente y pacta en la anterior legislatura

pero lo que se dijo verbalmente señor casanova no aparece hoy en la ley de turismo no aparece y si usted pactó con el pnv pídale cuentas al pnv pero no se las pida al partido socialista claro no me las pida a mí usted conmigo no pacto absolutamente nada le recuerdo que nosotros lo que hicimos fue tuvimos una posición crítica con la ley de turismo hicimos un apoyo crítico a aquella ley por lo tanto la propuesta que traía hoy el partido popular

al hilo de la posibilidad de crear ese órgano interinstitucional porque se habían dado esos desequilibrios

en la organización de eventos de congresos entre los territorios y usted tiene que saber

aquel ocho de junio de dos mil dieciséis bildu aprobó también una resolución por la que decía que se creara un órgano interinstitucional de coordinación para la celebración de congresos y de eventos si usted no fue fiel a los suyos trayendo aquí y pactando con el partido nacionalista vasco que no apareciera ese órgano interinstitucional en la ley de turismo

es usted usted hizo caso omiso del estudio que encargó bildu en el ayuntamiento de san sebastián cuando el alcalde del ayuntamiento

estaba en manos de bildu así que yo comprendo que usted tenga que hacer aquí un postureo

no señor casanova chapuza la suya por el trabajo que usted hizo con la ley de turismo por el trabajo que usted hizo

muchas y luego consiguió qué qué en coordinación con el sector no no se inventó el pacto con el partido nacionalista vasco sin contrastar con el sector si estaba de acuerdo o no en las enmiendas que ustedes habían pactado ustedes que estaban por la participación pero mire

vasco en materia de turismo tiene pendiente y está en ello para lo que es la creación del plan estratégico y el plan director de turismo y el consejero dijo en su momento no le veía perdone

en la comparecencia que tuvo lugar que iba a intentar que realmente ese plan director estuviera abocado y el objetivo era un desarrollo sostenible del turismo en euskadi por lo tanto eso es importante está ahí y eso es un compromiso del consejero y del gobierno vasco pero es que además en el turismo mice

es la desestacionalización lo que evita digamos la saturación de los destinos turísticos por lo tanto creo que no son incompatibles

en la medida de lo posible porque también es objetivo de los socialistas vascos que no haya saturación en los destinos al menos evitarlos poner los medios

las herramientas y los instrumentos para ello por lo tanto creo que con lo que hoy sacamos adelante se va a beneficiar ciudades no solamente las capitales sino muchas ciudades

medios y tienen establecimientos donde acoger esos eventos esos congresos no son solamente las tres capitales hay muchas ciudades alrededor de esas capitales que también tienen digamos los instrumentos para acoger y por lo tanto también para verse repercutidos en el impacto económico que el turismo de congresos

creo que la propuesta al menos a nuestro modo de entender es sostenible es posible y solventa y elimina susceptibilidades que hasta ahora se estaban dando

decirle simplemente que nosotros no compartimos en absoluto esa visión catastrofista que usted tiene

y de la realidad del turismo que existe hoy en día en euskadi este gobierno como el consejero lo ha reiterado en más de una ocasión

está trabajando y va a seguir trabajando por un turismo sostenible

documentos etcétera que ha anunciado la señora corcuera

concebidos redactados y desarrollados por el gobierno vasco casanova jauna falta de seriedad

eta zer esan duzu bai frivolidad en la medida en que estamos buscando una foto bueno

porque yo le pediría seriedad falta de chapuza y menos frivolidad a la hora de leerse el decreto de creación de la mesa de turismo del año dos mil quince

que se lo lea y luego a partir de ahí yo creo que se le aclararán muchas cosas la mesa de turismo es un órgano de cooperación coordinación y trabajo en común entre el sector privado y el sector público

pero el mismo decreto establece la posibilidad de crear grupos de trabajo permanentes y es uno de los que se ha creado efectivamente para tratar

que la propia mesa trate de la política turística en general de la misma manera que existe un grupo de trabajo sobre los apartamentos turísticos y lo que se decida en los grupos de trabajo en este caso del grupo de trabajo

donde está también el sector privado por lo tanto seriotasun pixka bat

eskerrik asko muy brevemente dos cuestiones

no vamos a entrar pero con respecto a las declaraciones del portavoz del partido nacionalista vasco

para ver que hay arquitectos y expertos en urbanismo que hablan de lo que yo he hablado y que tienen la misma visión sino real a veces vivimos en una dimensión paralela

estamos dispuestas a trabajar por un turismo sostenible y además

no solo para el turismo donde se centran las empresas por mucho que eso signifique la no saturación
de otros espacios gracias eskerrik asko garcía anderea

irakurri ezazu sinatu duzuen erdibidekoa el parlamento vasco insta al gobierno vasco a construir con carácter permanente la comisión de coordinación interinstitucional

y lógicamente bueno no se me ha respondido a nada de lo que he dicho anteriormente porque

si se presenta una propuesta sobre la coordinación interinstitucional en materia de turismo y se aprueba una transaccional que no tiene absolutamente nada que ver con ello

que a la mayor no se puede entrar hay que entrar a la descalificación personal o a la descalificación de la ley de turismo de cosas que han

que se traía una propuesta interesante y les decía estoy dispuesto a escuchar sin sectarismo me da igual que traiga la propuesta el pp el pnv o cualquier otro partido como se suele decir

la verdad es la verdad la diga agamenón o su porquero y si el pnv viene a traer aquí o el pp viene aquí a traer una buena propuesta veníamos a escucharlas y si el gobierno tenía que hacer o los partidos que sustentan al gobierno tenían que hacer una contrapropuesta

algunos tendrán necesidad de arrimarse a ciertos arboles para que les den sombra otros tenemos un proyecto lo suficientemente fuerte como para poder saber decidir cuándo queremos firmar y cuando no en función de que haya acuerdo político o no haya acuerdo político otros quizás como los toros cuando ya están moribundos buscan las tablas y buscan el cobijo

para algunos y para algunas sea el abrazo del oso hemos venido y hemos tratado de hablar de coordinación institucional para el turismo no hemos podido hacerlo

y todavía encima cuando se os ha puesto encima de la mesa esa evidencia

y hablando de cuestiones pasadas cuestiones pasadas que finalmente le quiero decir señora corcuera

que ya sabemos que su grupo trató de sabotear la ley de turismo lo sabemos

y trató de hacerlo no porque estuvieran en contra sino porque luego querían acusar al gobierno de tener una producción legislativa pobre

la posición unánime del sector del turismo

se nos instó encarecidamente a que esa ley de turismo se aprobara y a que dejáramos de lado las luchas partidistas para poder dar al turismo un instrumento que

y en ese sentido y no por ninguna necesidad ni particular mía ni de euskal herria bildu sino para responder a una demanda unánime del sector del turismo es por lo que tratamos

para fortalecer un modelo turístico propio en este país incluyendo defensas de los derechos de trabajadores que a ustedes también se les olvidó mencionar en esa ley si están en contra de la ley de turismo plantéesela a sus compañeros de gobierno plantéeselas a sus compañeros de gobierno si creen que es un mal instrumento es que ha dado usted a entender eso

proponga al partido nacionalista vasco que el gobierno presente

a su consejero y si la ley no es mala y si la ley es buena todo lo que usted ha dicho en referencia a la ley está de sobra y por supuesto que euskal herria bildu quiere un reparto equilibrado de los congresos ese es un problema que técnicamente estaría zanjado

y no tiene sentido que en el ámbito de la discusión de la coordinación global de políticas del turismo

a la petición de coordinación me plantean una mejora de la situación del turismo rural o de los agroturismos

pero es un aspecto absolutamente parcial que han utilizado para ocultar y para no dar el debate global que es el que se pretendía traer aunque el grupo proponente tampoco ha querido darlo yo sigo diciendo es frívolo que ante un sector económico con la importancia social de ordenación del territorio con todas las características que estamos no se afronten los debates como se deben afrontar y se busquen otro tipo de componendas que no están relacionadas con esta cuestión

se tratan dos aspectos diferentes y a los dos me voy a referir por una parte nos encontramos con la conciliación de la vida laboral y familiar y lo que desde las instituciones en nuestro caso desde el gobierno vasco pues podemos hacer para impulsarla y garantizarla y por otra parte también en esta iniciativa vamos hablar de la situación de las

del hogar y de la dificultad bueno del impedimento para poder acceder a estas

son los decretos ciento setenta y siete barra dos mil diez y treinta y uno barra dos mil quince los que regulan las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar ayudas dirigidas a compensar la disminución de ingresos que puedan producirse por dicha

ayudas que cumplen una doble función por un lado que aquellas personas que tengan menores o personas mayores a su cargo puedan acogerse a una reducción de jornada o puedan contar

y que para eso puedan tener beneficios para su contratación

para que puedan llevar acabo esto y también por otro lado porque la mayor parte de las que se acogen a estas ayudas son mujeres pues estamos hablando también de igualdad de conseguir la igualdad

y que puedan hacerlo con la ayuda y el impulso de las instituciones es decir este es el doble objetivo de estas ayudas que de manera unánime en este parlamento

decía la iniciativa de bildu en su parte dispositiva que cualquier trabajador o trabajadora de euskadi pueden acogerse a estas ayudas y hay que decir que no que no es así que se pueden acoger en función de las disponibilidades presupuestarias esta no es una partida

los trabajadores se podrán acoger o no con relación a estas ayudas queremos recordar aprovechando este debate que desde nuestro grupo hemos insistido

porque el dinero no llega y que por ello lo lógico sería cambiar el sistema reconocerlo como un derecho subjetivo y que se garantice la seguridad de que todos aquellos que quieran acceder a la conciliación de la vida laboral y familiar que puedan planificar su vida laboral en función de estas prestaciones pues que se lo permitan en la forma en la que están reguladas

porque creo que de verdad es una manera también de contribuir a la igualdad de las mujeres y con relación al colectivo que estamos hablando de esta iniciativa queda más claro si cabe

y por lo tanto hay que poner los medios para que puedan acceder a estas ayudas en igualdad de condiciones y por lo tanto que tengan igualdad de oportunidades

ese decreto pone de manifiesto que quedan expresamente excluidas aquellos que están en regímenes especiales

trabajadoras del hogar ya lo tuvimos lo tuvimos en febrero de este año allí pusimos de manifiesto cuestiones que hoy queremos reiterar aquí compartimos con el grupo proponente lo dijimos allí y aquí hoy lo confirmamos la situación precaria en la que se encuentra este colectivo en muchísimas ocasiones

aflore esa economía sumergida que todavía existe y en gran medida en este sector la necesidad de la mediación de lanbide difundiendo entre trabajadores y empleadores los respectivos derechos y obligaciones que tienen cada uno y allí se llegó a una enmienda de transacción en la que expresamente se recogía esa necesidad

y asimismo se solicitaba que a través de osalan y coordinando todas las áreas y departamentos del gobierno vasco implicados en la materia se elaborase un estudio que definiese la dimensión del problema y que recopilasen los pasos que se habían dado hasta la fecha

cuál eran las medidas que se podían adoptar desde las distintas actuaciones por lo tanto dentro de ese estudio y a través de ese trabajo de osalan perfectamente se puede y se debe lo que es la sustancia de esta iniciativa y que yo comparto que por eso la enmienda inicial iba en un sentido y el objetivo de esa enmienda yo lo comparto totalmente lo que ocurre es que que es lo que por eso firmo esta enmienda de transacción lo que pretendo que ese estudio

van a tener derecho a poder acceder a esas prestaciones las trabajadoras del hogar o no va a servir porque al ser un

es a lo mejor no derogar ese artículo sino establecer una fórmula diferente para que las trabajadoras y los trabajadores del hogar lo que pasa me refiero en femenino porque son mujeres sí puedan

no por el coste económico yo no me estoy planteando el coste económico en absoluto sino

que puedan porque es verdad y yo así lo comparto es una discriminación que con las medidas o con las

medidas que se puedan hacer y que legalmente sean posibles

en su caso puedan acceder a este tipo de prestaciones cuando están en las situaciones que tienen otros trabajadores de petición de excedencia como decía

por el cuidado de sus hijos o el cuidado de sus mayores y que de esta manera esta discriminación que en este momento exista

ver qué efectos no económicos sino qué efectos

de esa derogación se iba a conseguir el objetivo que yo

que todos creo que compartimos que se tiene que obtener y que en caso de que no sea así se planteen las fórmulas y se adopten las medidas
que se deriven de dicho análisis nada más muchas gracias eskerrik asko

andrea legebiltzarkideok egun on guztioi vaya por delante que desde el grupo parlamentario socialista compartimos diagnóstico y compartimos preocupación con el grupo proponente consideramos que es fundamental proteger y garantizar los derechos laborales y de la seguridad social

en el ámbito del hogar un colectivo compuesto en más de un noventa por ciento por mujeres y de las cuales el cincuenta por ciento

inmigrantes trabajadoras que en muchas ocasiones trabajan en condiciones precarias muy difíciles con una carencia absoluta de protección social un colectivo que durante décadas ha sufrido la desigualdad derivada de un fraude generalizado y extendido tolerado por desgracia con absoluta naturalidad por una sociedad que veía de lo más normal contar con una empleada del hogar sin ningún tipo de contrato por eso

allá por el año dos mil once quienes desde el gobierno aprobamos una legislación que hizo historia obligando a las personas empleadoras

en el hogar con independencia de la duración de su jornada de trabajo una legislación que garantizó

de las trabajadoras domésticas dignificando sus condiciones laborales y de alguna forma formalizando legalizando lo que hasta esa fecha era sinónimo de trabajo precario y en algunas condiciones de suma ilegalidad lamentablemente el gobierno de españa dio un paso atrás y a día de hoy

organización a la que pertenece españa pero cuya resoluciones y convenios parece

esos convenios sean ratificados en este país volviendo al hilo central del tema que nos ocupa reconozco la buena voluntad del grupo proponente en su petición

del decreto treinta y uno barra dos mil quince que excluirían al personal doméstico de acogerse a una excedencia o solicitar una revisión de su jornada laboral y como decía al principio puedo compartir

porque entiendo que sería de justicia y sería lo normal por tanto comparto el objetivo expreso la voluntad del grupo parlamentario socialista para seguir trabajando en aras de conseguir el objetivo que dentro de su propuesta pues en fin haya alguna serie de cuestiones que nos puedan generar dudas dudas en cuanto a la efectividad de la derogación que proponen en tanto en cuanto el personal doméstico se acoge a un régimen especial en el que probablemente los efectos de esa hipotética derogación

el efecto deseado o el efecto que nosotros queremos perseguir seamos pues o intentemos ser más prácticos y abordemos esta cuestión de manera más global el pasado dos de febrero este mismo pleno aprobó por práctica unanimidad una proposición no de ley en la que

sobre la situación de las empleadas del hogar en nuestra comunidad un estudio que me consta que ya se está elaborando que ya se está trabajando y que nos permitirá de manera más detallada

que en estos momentos tienen esas trabajadoras y esos trabajadores por tanto desde el grupo parlamentario socialista entendemos que es mucho más efectivo que la cuestión

su apartado específico en dicho estudio y se valore no solo las consecuencias de la derogación que ustedes nos proponen sino la vía y las medidas a poner en marcha para poder equiparar las condiciones laborales del personal doméstico a otras equiparables y que ya están reflejadas en el régimen es decir no solo de manera precisa en esta cuestión sino de manera global vamos a intentar que a pesar de que esas trabajadoras y esos trabajadores

pueda equipararse a las condiciones a las prestaciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras del régimen general por tanto una vez tengamos

a trabajar en la mejora de las condiciones laborales y la consecución como decía de una plena igualdad en las condiciones laborales de las trabajadoras del personal doméstico

eguerdi on denoi nos trae la señora etxebarrieta esta proposición no de ley pero antes de entrar al

a ese anterior debate de pleno de dos de febrero iniciativa de elkarrekin podemos sobre garantías de derechos de trabajadoras del hogar nosotros calificamos hicimos una calificación sobre esta cuestión sobre el trabajo de estas personas

en ese momento nos parece un trabajo imprescindible para nuestra sociedad pero a la vez nos parece que está infravalorado y

creo que en ese debate observamos un objetivo común en la globalidad de los grupos observamos ese impulso por

del colectivo de trabajadoras del hogar y su visibilidad y en el ámbito de la garantía de los derechos incrementar su seguridad y salud laboral

desarrollado la señora llanos en relación al acuerdo y las partes del acuerdo en cualquier caso objetivo compartido aquel día y una pequeña cosa a subrayar la calificación de ese acuerdo desde nuestro

en defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar a nuestro juicio

otra cuestión una cuestión también relacionada con este colectivo aunque es anterior a la cuestión es registrada con anterioridad a la cuestión planteada por

exclusión como dice usted de este colectivo de algunas prestaciones y en concreto la exclusión a su juicio que se recogen en los artículos catorce punto tres del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez

del decreto treinta y uno barra dos mil quince y usted para superar esta cuestión nos plantea

estos artículos eso es lo que plantean yo no niego su buena voluntad pero nosotros vamos a ser muy críticos con esta pnl con esta proposición no de ley por qué

usted confunde exclusión con señal con indicación en qué sentido

usted va por una carretera y se encuentra con que esta carretera está cortada por un gran desprendimiento

lo que usted nos plantea aquí es lo siguiente quito la señal ya no existe el problema eso es lo que usted nos está planteando

ha solucionado usted el problema la realidad no es así señora etxebarrieta

la carretera va a seguir cortada y el desprendimiento mientras no

y por qué le digo esto porque lo que hay que hacer es analizar toda la realidad normativa no solo esos dos artículos que se suspendan esos dos artículos

avance no significa ningún avance por qué porque la exclusión a la que usted hace referencia no está en ellos

la exclusión no está en ellos dónde está la exclusión la exclusión para entender la exclusión

a un poco antes del dos mil doce antes del dos mil doce el colectivo se integraba en el régimen especial de la seguridad social

de empleados del hogar o lo llamaban así la ley estatal veintisiete barra dos mil once tiene una disposición adicional que es la treinta y nueve

se integrará este régimen especial de seguridad social en el régimen general de seguridad social aparentemente si dejamos de leer ahí esa disposición

estamos en presencia de trabajadores por cuenta ajena pero no termina ahí la disposición porque la disposición lo que dice es que lo integra mediante un sistema especial un sistema especial que no se corresponde en su totalidad con el de los trabajadores por cuenta ajena por ejemplo en grandes ámbitos difiere el ámbito de la incapacidad temporal por ejemplo

el ámbito del desempleo por ejemplo además de esta cuestión referida

de trabajo de las empleadas del hogar están conceptuadas como relaciones laborales de carácter especial es legislación laboral

legislación competencia exclusiva del estado modificar la relación laboral especial y llevarla hacia la regulación que tienen los trabajadores por cuenta

competencia del estado además de estas dos cuestiones relacionadas con régimen de seguridad social y con relaciones laborales

atendiendo a cuestiones como la prestación de servicios de cómo se prestan los servicios

continuo o discontinuo prestándoselo a uno o a más empleadores ahí está la cuestión ahí está lo que usted dice la

no en la señal no en los artículos quitando la señal usted podrá obtener un bonito titular mañana

consigue algo en defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar le adelanto esta respuesta nada nada

menos que nada porque consigo lo mismo que en el símil si usted quita la señal crea una situación de peligro en este caso qué crearía usted crearía crearía léase las normas una expectativa falsa

esto se llama irresponsabilidad señora etxebarrieta qué proponemos nosotros

en aquel acuerdo esta cuestión ya que no es una cuestión de prestaciones sociales no es una cuestión de prestaciones sociales es una cuestión de regulación laboral

permite esta inclusión y esta inclusión mejoraría sustancialmente ese acuerdo sin ninguna duda por lo cual yo le animaría a votar favorablemente

transado de hecho entiendo que no se podrían negar a votar este texto señora etxebarrieta

no vaya por ahí quitando irresponsablemente señales eskerrik asko

decir bueno ya se ha dicho desde luego desde nuestro grupo desde nuestra coalición decidimos en su día ni tan siquiera enmendar la iniciativa porque es una iniciativa que viene de las propias trabajadoras del sector que son las

y que así además nos lo habían hecho saber tanto a través

que esta es una de sus reivindicaciones y por lo tanto nosotros en primer lugar

ni tan siquiera enmendar a riesgo de quedarnos ligeramente al margen del debate porque nos parecía muy importante que se aprobase

la iniciativa y que no se intentase hacer juego político

no sé si hace falta repetir las características precarias del sector al que nos estamos refiriendo pero bueno brevemente sí que lo voy a hacer porque es un sector en el que las trabajadoras sufren la precariedad en primer lugar por las propias características

pero además por esa condición especial de la que se ha hablado aquí que hace que entre otras cosas la tutela o la vigilancia

no sea tampoco la misma que la que se puede o la que se hace sobre otros sectores de trabajadores esto es un hecho además que ellas han denunciado ya en esta cámara en anteriores ocasiones

ha sido resuelto pese a algunos lentos avances que sí ha habido en las condiciones de trabajo de este sector también ha habido retrocesos y algunos se han indicado entre ellos pues el que realizó el partido popular

también se hablado de él aquí nosotros planteamiento que hacemos creemos que sencillamente hay que aprobar esta iniciativa porque se trata de trabajadoras asalariadas y como tal entendemos que deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadoras y trabajadores asalariados independientemente de que su trabajo sea o no generador de plusvalía y en definitiva que estos trabajos pertenezcan a la parte reproductiva o la parte productiva del sistema porque seguramente

radica el origen del problema de fondo un sistema capitalista en el que las labores reproductivas ocupan un papel subsidiario respecto a las labores productivas

la dedicación femenina al trabajo de la reproducción en nuestra opinión no es una cuestión biológica sino que es el resultado de una construcción social que aumenta las diferencias de género y convierte a las mujeres en sujetos orientados fundamentalmente al trabajo de reproducción y a los hombres centrados básicamente al trabajo de producción

merece ser valorado y cuantificado y por ello independientemente de que el empleador sea una empresa o un particular independientemente

estas trabajadoras que trabajan y que trabajan con un contrato de trabajo deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadores

directamente con los derechos laborales a los que se ha referido el señor aiartza la legislación laboral que efectivamente no es competencia nuestra pero también en las relacionadas en las ayudas a los trabajadores y de eso es de lo que estamos hablando

está hablando de ayudas que da el gobierno vasco a trabajadoras y trabajadores esa es la propuesta y eso es competencia de este parlamento en esta ocasión no vale

echar la culpa a madrid nosotros la cuestión

socialista de euskadi las compartimos ya los saben las compartimos en esta cámara creo que casi todos

que no las ha llevado a cabo en el gobierno de madrid de hecho es una de las primeras cosas que nuestro grupo en el congreso unidos podemos a través además de una parlamentaria

hizo en esta legislatura presentar una pnl para instar al gobierno

pero ustedes han presentado esto para desviar la atención para que no debatamos

y entiendo que porque el gobierno a través de ustedes de los grupos que lo sustentan pues no está dispuesto en estos momentos a abordar esta cuestión

muy claro en nuestro grupo porque no estamos aquí debatiendo de cuestiones de legislación laboral no no estamos hablando de un decreto que plantea establece las ayudas las ayudas para las personas trabajadoras que se acogen a la conciliación de la vida laboral y familiar

pero la ayuda la da el gobierno el gobierno vasco y la puede dar perfectamente y si no la puede dar por qué razón ustedes plantean

es una cuestión de voluntad política nosotros pensamos que las razones por las que el gobierno no está dispuesto a avanzar en esta cuestión entendemos igual luego me corrigen o igual se me escapan otros motivos

pensamos que es una cuestión de prioridades económicas y que el hecho de que estas personas trabajadoras puedan acceder a estas ayudas

del gobierno esa es la única razón que nosotros entendemos que pueda llevar al gobierno a haber presentado una enmienda que habla de otra cosa

que es perfectamente compatible en una misma iniciativa con lo que proponía el grupo de eh bildu y que como decía nosotros teníamos pensado apoyar y hay otra cuestión que desde mi grupo no entendemos

que habíamos visto que había hecho una enmienda que en realidad era muy parecida a la de eh bildu pues finalmente ha transaccionado con ustedes y de lo que ellos proponían pues realmente no queda nada

muy muy parecida con el grupo proponente y que si hubieran querido

y desde luego mi grupo si el contenido hubiera sido ese pues lo hubiera apoyado y yo soy al primero al que le da repelús cuando tengo que votar cosas

pero sí el contenido era ese que es el que buscan además las trabajadoras pues lo hubiéramos apoyado estamos hablando

a trabajadores y trabajadoras y de las que ha excluido o de las que se excluye a un sector concreto de trabajadores y trabajadoras sobre todo trabajadoras como hemos dicho

de que no están completamente integradas en el régimen general de la seguridad social porque en realidad hoy en día sí están en el régimen general pero con una situación especial y eso en nuestra opinión es solo una excusa porque es una ayuda que da el gobierno vasco y por lo tanto perfectamente la puede dar a mí el símil que ha utilizado usted señor aiartza la verdad he intentado comprenderlo y no sé yo no era el más listo de la clase tampoco el

que es el de unas ayudas sociales a trabajadoras y trabajadores para que concilien la vida familiar

pueden pasar ustedes excepto las trabajadoras domésticas

pues es efectivamente es quitar esta señal y que todas las trabajadoras que cumplan los requisitos

a estas ayudas por eso nosotros como he dicho al principio vamos a apoyar la iniciativa vamos a utilizar nuestros once votos en esta cámara

y no vamos a apoyar la enmienda que proponen ustedes porque creemos que ha sido utilizada como cortina de humo creemos que no quieren

no abordar esta cuestión en estos momentos y pensamos que es una manera de ganar tiempo y no abordar el debate y sabemos además que

están de acuerdo también con esta posición y eso al menos para nosotros también es de vital importancia eskerrik asko eskerrik asko hérnandez jauna

pues puedo mirarles a todos y desde el escaño es más complicado bien me voy a referir en primer lugar al señor hernández

por parte de su grupo en alguna otra ocasión se han dirigido a nosotros para llegar a un acuerdo

que usted dado el repelús que le da votar con nosotros o acordar con nosotros si tenemos una iniciativa conjunta

yo creo que para estereotipos los suyos pero en fin con relación

pero yo he dicho en la anterior intervención y ahora me referiré cuando

hay cuestiones que se pueden plantear que no nos podemos coger solo la bandera de que es legislación estatal y entonces aquí no podemos hacer nada en ese sentido

decidirlo allí pero que aquí poniendo

ese objetivo lo podremos conseguir igual yo se lo he dicho antes

a favor del objetivo a conseguir es verdad que yo hablé con el señor andueza porque me mandó una propuesta de iniciativa

en la que es verdad que nada tenía nada que ver con la original porque

un asunto concreto y la enmienda que en un principio se había propuesto de totalidad era más de

sí que era una enmienda mucho más concreta yo sí que hablé que se la podía mandar que si quería añadir algo o podíamos llegar a un acuerdo y yo además dije bueno si yo ese acuerdo puedo no firmarlo pero lo iba a votar igual si se hubiera llegado a un acuerdo más amplio porque

los que hemos redactado la enmienda lo compartimos estamos de acuerdo con el objetivo

nos podemos ir de aquí diciendo sí se han derogado esos dos artículos pero con la derogación de esos dos artículos acabaríamos con la discriminación

entonces qué se trata de salir de aquí todos encantados pero luego

la cuestión es que se analice que se analice dentro de ese estudio si con la derogación de esos artículos ya directamente esa discriminación desaparece

de que no desaparezca que se estudie la fórmula a través de una modificación distinta a través de una regulación diferente para que las trabajadoras del hogar también puedan acceder a esas ayudas de conciliación y además yendo a más allá en mi enmienda lo he dicho aquí y

lo que decía la conciliación de la vida laboral y familiar sobre todo para

debe de ser un derecho subjetivo no puede estar siempre pendiente de las disponibilidades presupuestarias y de que el primero llega es el primero que tiene derecho a esa ayuda entonces en esa cuestión quería aprovechar las dos cosas para que no solamente las trabajadoras del hogar sino cualquier trabajador o trabajadora vasca no esté pendiente de que tiene que presentarlo el primero para que no se acabe el dinero y que en cualquier momento del año pueda poder acceder a esas ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar ese era el objetivo y yo lo comparto totalmente con usted y creo que es más

pero sí que tiene más visos de que realmente podamos conseguirlo a través de esta enmienda que hemos firmado

señora etxebarrieta pues sí es cierto que es una pena que no hayamos podido llegar a un acuerdo

todos hemos hecho un esfuerzo lo hemos intentado al final no ha sido posible creo que la meta la compartíamos

lo que sí espero es que durante este tiempo encontremos un camino en el que cruzarnos en el que compartir y llegar juntos a esa meta yo por lo menos tengo esa

que está elaborando osalan como decía en mi anterior intervención tengamos una visión global y podamos detectar carencias

solucionar estos problemas por tanto en fin creo que

que tarde para encontrarnos en ese camino y llegar a esa meta a ese objetivo común que creo que todos los aquí presentes compartimos al señor hernández en fin a ustedes en cuanto no se comparte ese camino

se lo decía ahora a la señora etxebarrieta compartimos meta no compartimos el camino hay voluntad política por supuesto que hay voluntad política y sobre todo

el que permitió que a las personas empleadoras se les obligara a tener que hacer un contrato a todas las empleadas del hogar independientemente de las horas que desempeñaran su trabajo en fin creo que nosotros

a echarnos un discurso doctrinario que ese discurso doctrinario nos lo repita tres veces

empiecen por su casa que hay algún empleado doméstico en aragón que tuvo que esperar un poco de tiempo para que tuviera algún contrato en casa de algún compañero de su partido pues bueno pues empiecen por ahí en fin

aquí el movimiento se demuestra andando y se demuestra con los hechos pues empecemos cada cual por su casa yo en mi casa

tengo la conciencia muy tranquila de lo que hicieron los míos porque creo que el acuerdo

es un antes y un después en los derechos laborales de este país y especialmente en los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar y creo que todos españoles no españoles en sentimiento debemos de cumplir con esa legislación por tanto como decía

por su casa y termino diciendo pues lo que decía al principio que ojalá ese estudio arroje

y lo podamos recorrer juntos para solucionar los problemas las carencias y en definitiva para poder solucionar el problema de desigualdad que yo comparto siguen teniendo

eskerrik asko señora etxebarrieta no quiero que se vaya con pena
no se vaya usted con pena no se tiene que ir con pena

tampoco le he mandado a ningún sitio tampoco le he mandado a ningún sitio he dicho que hay que comprender entender la legislación en su globalidad

el hecho de que yo no quiera que se vaya usted con pena no quiere decir que yo no vaya a decirle las cosas como a mi entender son como a mi entender son

y la iniciativa es suya esta conversación también podíamos haber

cómo veo yo esta cuestión cómo vemos nosotros esta cuestión bien después de eso dice usted el tono

porque me preocupa porque me preocupa lo que se puede crear con esto y no solo lo sufriríamos nosotros lo sufriría usted también me preocupa mucho

y luego sobre el ceñirse a la cuestión usted nos plantea una proposición no de ley estrictamente jurídica

estrictamente jurídica que se suspendan automáticamente estos dos artículos estrictamente jurídica lo que nosotros hemos hecho

qué ocurriría en estos casos qué ocurriría en estos casos y lo que le he contado antes de la señal es lo que ocurriría es lo que ocurriría no conseguiría usted se lo puedo decir usted con el tono que usted quiera no conseguiría usted ni medio metro me he ceñido exclusivamente me he ceñido exclusivamente a la cuestión que usted plantea señor hernández me he ceñido exclusivamente a la cuestión que se plantea en la iniciativa

pueda parecer qué es del ámbito políticas sociales es una cuestión esencialmente del ámbito laboral y lo que se está planteando

desde el dos de febrero desde ese acuerdo es

para avanzar en esta cuestión la señora llanos me echaba una diciendo es que ustedes siempre se escudan no no nosotros no nos escudamos en qué es normativa o qué es competencia exclusiva del estado la regulación laboral no

de ese estudio también puede salir que a mi juicio saldrá sobre esta cuestión en primer lugar que es irrelevante que hagamos desaparecer estos artículos saldrá en primer lugar a mi juicio eso pero en segundo lugar

qué pasos hay que dar en otras cámaras con lo cual me he ceñido a la cuestión señor hernández y en esas cámaras ustedes tienen

en esas cámaras es donde se tienen que retratar no solo en esta también en aquella porque yo comparto lo que ya compartíamos el dos de febrero

referidas a este tema yo comparto que ese tránsito que da esa disposición treinta y nueve esa disposición adicional treinta y nueve de esa ley es un tránsito por decirlo así injusto

pero lo da y esta ahí a medio camino

ni lo que muchos entendemos que tienen que ser pero evidentemente si leemos la reglamentación la regulación en este sentido son lo que son y las exclusión vuelvo a repetirle está y la exclusión señora etxebarrieta y perdóneme que me ponga muy pesado está no está en la señal de esos dos artículos haga el ejercicio por favor

y verá como le sale la excepción ustedes van a tener mucho que decir en esta cuestión díganlo díganlo no venga aquí en esta posición que este discurso que también el señor andueza

ha subrayado que ha hecho para luego en otros ámbitos no dar ese paso tan valiente que este dan allí es donde se puede avanzar mucho también

que una cosa es que yo diga he utilizado quizás una expresión vulgar pero que me da repelús llegar a acuerdos

por cuestiones ideológicas y otra cosa es que y lo he dicho en mi anterior intervención si nosotros estamos de acuerdo con ustedes en algo concreto y además se ha visto en esta cámara no tenemos problema

usted por eso y de hecho por eso yo me he referido en mi intervención que su enmienda era muy parecida

propuesta de eh bildu y por lo tanto creo que

si ustedes se hubieran puesto de acuerdo nosotros por el contenido con el que estábamos de acuerdo

votado yo creo que no ha hecho en absoluto ningún discurso doctrinario ni tampoco le he negado al partido socialista lo que haya podido hacer

se han hecho algunos avances y algunos retrocesos que tienen más que ver con el partido popular

socialista pero sí me reitero en que creo que es una cuestión de voluntad política

sino porque entiendo y he argumentado que creo que cuando ustedes presentan una enmienda en la que se habla de otra cosa

que ratifique en el acuerdo de la oit y no recogen nada de la enmienda inicial creo y lo he dicho que lo están haciendo porque el gobierno actual el gobierno vasco no está

que es que este colectivo trabajador se pueda acoger a estas ayudas creo que eso no es ningún

ideológico y sí yo reconozco que a mí soy una persona bastante ideologizada pero creo que

en ningún sentido doctrinario en absoluto y nosotros nos reiteramos en que no es una cuestión de normativa laboral son unas ayudas que da

y por lo tanto en nuestra opinión esos puntos de los decretos se pueden eliminar perfectamente y estas personas

receptoras de estas ayudas si cumplen los requisitos porque estas trabajadoras aunque tengan una relación laboral especial definida así por el estatuto de los trabajadores

pero tienen contratos de trabajo y tienen derecho a las medidas de conciliación

a excedencias exactamente igual que el resto de trabajadores eso sí es legislación laboral a lo que no tienen derecho es a las ayudas que da el gobierno vasco y eso no es legislación laboral señor aiartza y yo pues no soy abogado pero creo que está muy claro y si no es así y además todos los grupos han mostrado voluntad en esto yo espero que el gobierno vasco a la mayor brevedad haga lo que cree que tiene que hacer pero no lo va a hacer en estos momentos ustedes hubieran llegado a un acuerdo transaccional con ellos para que según la manera que ustedes creen que se tiene que hacer esto se hubiera hecho pero eso no es verdad y por eso yo me reitero

pienso que es una cuestión simplemente económica pues que en el gobierno ahora no está entre sus prioridades tomar medidas en este sentido

alto además que es el hecho de que estas personas puedan acogerse a estas ayudas besterik ez eskerrik asko

elkarrekin podemos presenta esta iniciativa en el marco de la voluntad decidida de este grupo parlamentario por dar un impulso mayor a las políticas de igualdad y contra las violencias

para ello trabajamos en la elaboración de iniciativas que promuevan políticas y medidas integrales y transversales en todos los niveles institucionales y sociales

que ponen el foco en una medida que viene funcionando desde la aprobación de la ley orgánica

con el fin de acabar con esta lacra extendida en nuestra sociedad y que atenta directamente contra los derechos humanos y la dignidad y la vida de las mujeres esta semana de nuevo indignación

el asesinato de un niño de once años perpetrado por un hombre

de la que llegó a tener una orden de alejamiento en euskadi la última semana

este parlamento emitimos una declaración como consecuencia del feminicidio

de doce años estos episodios estos datos lejos de paralizarnos nos obligan a redoblar esfuerzos en todos los ámbitos de nuestras vidas

queremos un parlamento y un gobierno que den señales claras inequívocas más allá de declaraciones decididos

las políticas de prevención y actuación ante la violencia machista cuya erradicación debería ser una de las prioridades absolutas de cualquier fuerza política

la unanimidad de este parlamento es una señal en este sentido lo celebramos y reconocemos la disposición de todos los grupos para llegar a este acuerdo las medidas que impulsemos a través de esta y otras iniciativas deben atravesar todas las políticas desde el impulso a las políticas educativas en igualdad la de desarrollo económico sociales empleo justicia trabajo seguridad hasta el fortalecimiento y creación de estructuras para la participación

implementación y evaluación de los protocolos de actuación además en cuanto a las medidas ya existentes consideramos que es preciso reducir las trabas legales y burocráticas

de los recursos sociales necesarios para garantizar su integridad física facilitar su autonomía personal y apoyar un proyecto

esto último es lo que queremos impulsar con esta iniciativa las mujeres cuyos derechos humanos han sido vulnerados de forma cotidiana sistemática y reiterada

sin titubeos y sin fisuras con medidas específicas que pongan en el centro de la política a la mujer sus necesidades

sus fortalezas y potencialidades las mujeres que sobreviven a esta grave vulneración de derechos tienen que afrontar las marcas que la violencia ha dejado en todas las dimensiones ámbitos y aspectos de su vida además de serios daños físicos los más visibles pero la violencia también puede generar

miedo estrés conmoción psíquica aguda ansiedad y desorientación sentimientos de subordinación dependencia y sometimiento sentido de culpabilidad incertidumbre

estas mujeres tienen poco o nulo margen en la toma de decisiones con lo que respecta a su vida propia también sufren trastornos del sueño interiorización del machismo dependencia del varón y en general de todas las figuras de autoridad

de los daños sufridos a nivel físico pero también a nivel de autoestima psicológico emocional económico patrimonial sexual en definitiva

en los que impacta de forma profunda la violencia de género se trata de emprender un nuevo proyecto de vida

en numerosas ocasiones con hijos e hijas menores de edad a cargo los cuales también son víctimas y están profundamente dañados y para ello es fundamental

en relación a la violencia contra las mujeres afirmaba la ley integral no aborda el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género que debería incluir entre otras cuestiones

adecuada y garantías de no repetición doce años después la falta de compromiso con las víctimas supervivientes es una asignatura pendiente y no abordada

tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección en este marco vamos a la transacción que este parlamento aprobará

en el primer punto se insta al gobierno vasco a estudiar y revisar y esperamos que en consecuencia se realice también una modificación de los requisitos para acceder a la prestación

en la justificación de la iniciativa que presentábamos planteábamos que la orden veintinueve de octubre de dos mil catorce del consejero de empleo y políticas sociales que regula dicha prestación

y desdibujan el motivo central por el que las mujeres deberían acceder al mismo que no es otro que la violencia vivida los requisitos para la concesión y pago de la ayuda son estos

b carecer de rentas que en cómputo mensual superen el setenta y cinco por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias en la forma prevista en el artículo cinco de la orden cien tener especiales dificultades para obtener un empleo que se acreditarán a través de un informe emitido por lanbide servicio vasco de empleo destinar la ayuda a paliar temporalmente la ausencia de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación e no haber sido beneficiaria

f acreditar la situación de violencia de género en la forma prevista en el artículo siguiente no habiendo transcurrido más de un año entre la entrada en vigor de las medidas de protección y la fecha de solicitud de esta ayuda g no convivir con el agresor ni seguir manteniendo relaciones de pareja con el mismo h no hallarse sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas y no estar incursas en alguna prohibición legal que las inhabilite para ello

tributarias y frente a la seguridad social según lo establecido en la normativa vigente realmente pensamos que esta orden

revisada y modificada para ampliar y facilitar el acceso de las mujeres a un apoyo económico temporal

como una referencia de mínimos a partir de la cual desarrollar normas que mejoren garantías

además a través de iniciativas como esa tenemos la oportunidad de continuar construyendo y promoviendo un sistema de atención que implemente de forma sistemática y estructurada medidas de reparaciones específicas para las víctimas de violencias machistas aspecto

de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el punto siete de esta transacción aun sabiendo que las modificaciones a introducir en la implementación de las prestaciones se definirán a partir del estudio y revisión que se proponen en esta transacción vamos a compartir brevemente opinión y propuestas sobre algunos de los requisitos que establece el decreto sobre el primer requisito entendemos que cualquier mujer en proceso de salida de una situación de violencia

que se encuentre en nuestro territorio ya sea por vínculos anteriores por vínculos actuales por relaciones de confianza porque surge un nuevo empleo en definitiva por el motivo que fuera las redes sociales o familiares mínimas necesarias para instalarse y emprender un nuevo proyecto de vida

sobre el tercer punto el que establece que la mujer debe tener especiales dificultades para obtener un empleo y lanbide servicio vasco de empleo acreditarlas realmente

entendemos que las especiales dificultades son indudables e incuestionables el proceso de salida de una situación de violencia

siempre un lastre una dificultad añadida para la búsqueda y todo lo que exige la misma independientemente de la edad el nivel de preparación general o especializada las circunstancias especiales que está viviendo por sí solas deberían considerarse como un factor determinante en el proceso de mejora de su empleabilidad sobre los dos últimos requisitos los que hacen referencia a no estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones y encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias

sobre las vías que se establecen para acreditar la situación de violencia es un tema complejo lo sabemos pero no imposible de revisar y resolver

por los servicios especializados y profesionales como para generar más y mejores mecanismos de acreditación que sean facilitadores y garantistas la orden de protección

excluye del apoyo a las mujeres que no está preparadas para iniciar un proceso judicial

o que deciden no iniciarlo nunca desde nuestro punto de vista lo realmente importante imprescindible y central para la puesta en marcha de toda la batería de medidas de atención

debería ser la iniciativa de la mujer de poner en conocimiento en cualquier organismo sean servicios sociales justicia servicios de salud policía educación etcétera

existir los procedimientos y protocolos interinstitucionales para atender proteger y acreditar esa situación sin que la denuncia se convierta en requisito

estas son algunas de las ideas que haremos llegar al estudio y revisión que aprobamos por unanimidad hoy en esta cámara

respecto a la rgi y a la prestación complementaria de vivienda si se hace un análisis

requisitos órdenes y procedimientos se puede concluir que claramente ponen en mayor riesgo a las mujeres que están en situación de exclusión social seguimos con preocupación también lo que nos trasladan los colectivos sociales acerca de la atención que lanbide presta a las mujeres en cuanto a la privacidad confidencialidad etcétera la lectura generalizada actual

no garantiza una alternativa en caso de violencia machista es por eso que nos pareció muy pertinente incorporar la propuesta que

a las mujeres víctimas de violencia en esta intervención mencionamos también especialmente el punto diez de la transacción

denomina para la erradicación de la violencia contra las mujeres para la prevención detección precoz

atención y reparación del daño a niños niñas y adolescentes víctimas de violencia machista la realidad en las dos últimas semanas lamentablemente nos ha demostrado una vez más que los menores de edad a cargo de mujeres víctimas de violencia por parte de parejas o exparejas también son víctimas y están expuestas a un alto nivel de riesgo

que ha permanecido invisible por años y promulgar medidas claras a este respecto por último queremos destacar los puntos que hacen referencia a la participación tanto de mujeres que han accedido a las prestaciones como de agentes instituciones

etcétera imprescindible para asegurar que llevamos adelante procesos que observen y recojan toda la complejidad los saberes acumulados la experiencia

reconociendo una vez más la voluntad de este parlamento por llegar a acuerdos en este tema central para mejorar la vida de las mujeres eskerrik asko eskerrik asko arana

estatuaren mailan indarrean dagoen legea aldatzeko abordamos un tema de actualidad como es la violencia de género tenemos también que poner a colación los últimos episodios de violencia

obviamente vuelven a poner de manifiesto que estamos ante una auténtica lacra y uno de los principales problemas de esta sociedad quería destacar inicialmente el acuerdo por unanimidad también el esfuerzo de todos los grupos y sobre todo la satisfacción de este grupo porque los dos

puntos que recogíamos en nuestra enmienda presentada en la propuesta

en la enmienda de transacción acordada decía que

se ha iniciado a nivel estatal con el pacto de estado contra la violencia de género suscrito en el congreso de los diputados precisamente además que ha posibilitado

poder llegar a un informe sobre un diagnóstico de la situación y con medidas concretas

las múltiples deficiencias que también tiene la ley integral de violencia de género de dos mil cuatro hainbat arlo aztertu behar dira bai

hartu behar da consideramos que hay que incidir en distintos aspectos como son las causas las respuestas las medidas los servicios

de las que hablamos en alguno de los debates anteriores la prevención la protección en los distintos ámbitos la protección de estas mujeres

porque tenemos datos de cómo se pone en evidencia que muchas mujeres interponen denuncias y luego se retiran un quince por ciento

casos en los que interponen las mujeres denuncias luego estas se retiran y creemos además que es importante esa atención integral que aborde también la situación de los menores

propuestos por el partido popular por lo tanto aparte de entender que en relación a la orden

esta orden lo cual nos parece unos términos más adecuados que son los que aparecen en la enmienda de transacción

a una enmienda de transacción también aprobada por unanimidad la pasada legislatura por todos los grupos en la comisión de empleo y asuntos sociales y como decía satisfechos porque

y promover actuaciones de sensibilización prevención y protección encaminadas

y también otra de las cuestiones que hemos reivindicado desde el principio de esta legislatura que es que se remita a esta cámara a la mayor brevedad posible para su tramitación el proyecto de ley para la erradicación de la violencia de los géneros orduan

muchas gracias presidenta el grupo

modificación de prestación de pago único a mujeres víctimas de violencia de género

proponente planteaba modificar los requisitos que se exigen para proceder a abonar estas prestaciones de pago único a las víctimas de violencia de género aunque luego no explicaba muy claramente cuáles eran los requisitos que a su juicio había que retirar consideraba que no eran adecuados hoy la señora arana lo ha explicado en su intervención en un poco más de profundidad

es del veintinueve de octubre del dos mil catorce es decir de hace dos años desde luego mi grupo parlamentario considera que las víctimas han de contar con el apoyo necesario para poder emprender un nuevo proyecto de vida que es fundamental

para conseguirlo además de las cantidades económicas que lógicamente también son importantes contar con ellas para poder iniciar esa nueva vida no se puede poner en cuestión la voluntad de todos los partidos políticos de esta cámara

contra esta lacra social de la violencia de género seguimos conociendo casos continuamente y es importante

en todo lo referente a la protección a las víctimas de violencia de género yo desde luego hoy siento satisfacción en este

todos los grupos parlamentarios creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante a la hora de juntar todo y acordar una enmienda transaccional muy completa que ha venido a recoger y a recopilar lo que habíamos ido aportando en las diferentes

parlamentarios dentro de esta enmienda

que siendo el tema de la importancia y de la relevancia que tiene creo que este esfuerzo ha merecido la pena y hemos logrado

y eh bildu y votará a favor de ella aunque no la ha firmado el grupo popular es una enmienda transaccional amplia que primero hace referencia

del dos mil catorce del consejero de empleo y políticas sociales y que han de cumplir las mujeres que han padecido violencia machista por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por alguna de afectividad aunque no exista esa convivencia para poder acceder a esta prestación económica de pago único también contar en este proceso para el estudio revisión de la orden con la participación activa de todas las administraciones públicas en la materia que pueden

y además otra serie de colectivos de atención a mujeres víctimas de violencia de género o feministas o incluso dentro del ámbito sanitario judicial que pudieran también aportar a esta cuestión lo que considerarán pertinente también para

también que han accedido a esas prestaciones que también es importante

a la renta de garantía de ingresos prestación económica así como la obligación de proveer los medios de vida para hijos e hijas

entre otras acciones solicita que se envíe a este parlamento

los informes y estudios que se mencionan en la enmienda transaccional

la rgi a mujeres víctimas de violencia de género aprobada

y concretamente también la sistematización sobre la coordinación de lanbide con otros departamentos del gobierno vasco que es

afecta a diferentes departamentos y

específica por parte del gobierno vasco también hace referencia a la necesidad de

encaminadas a erradicar esta violencia machista a remitir el proyecto de ley de erradicación de la violencia contra las mujeres a la mayor brevedad posible y además incluir dentro del mismo medidas concretas de reparación y reconocimiento social de las víctimas impulsar también esa eficacia y eficiencia en materia de atención a víctimas de violencia de género a través de esa coordinación interinstitucional que es fundamental establecer planes de detección precoz a la atención a violencia machista y también en concreto referente también

a la reparación de daños a niños niñas y adolescentes víctimas de violencia de género los cinco últimos puntos vienen a recoger

entre el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista en nuestra enmienda a la totalidad y el resto también aglutinado como he dicho los puntos incluidos en las distintas iniciativas de los diferentes grupos estas medidas en su conjunto facilitan mucho más a las víctimas

amplia y concreta y que va en la línea de lo incluido dentro del convenio del consejo de europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica denominado convenio de estambul de once de mayo

dos mil catorce los fundamentos de ese convenio son fundamentalmente del de prevenir la violencia proteger a las víctimas sensibilizar a la sociedad

de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa en tercer lugar destacar la importancia de la actuación

y por último la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer todos estos fundamentos que como he señalado recoge este convenio han sido plasmado también dentro de esta enmienda

que hoy hemos firmado y ya en el pleno del veintitrés de febrero de este año aprobamos una enmienda transaccional firmada por el grupo nacionalista vasco el grupo socialista el grupo eh bildu y elkarrekin podemos y con el voto a favor

para la inclusión dentro del calendario legislativo de la elaboración de un proyecto de ley de erradicación de la violencia contra las mujeres en la enmienda transaccional de hoy se solicita remitir este proyecto

posible a esta cámara para su tramitación y además incorporar en esa nueva ley

medidas concretas de reparación y reconocimiento social de las víctimas

va a permitir dar pasos adelante en la protección a las víctimas de violencia de género lo cual creo que siempre es positivo y además como he dicho es muy completa y que recoge todas las propuestas de los diferentes

guri ere zehaztasun hori lortzea kostatu zitzaigun en esta proposición se exige el cambio de requisitos para las solicitantes de dicha prestación siendo el objeto de la misma la concesión y el pago de la ayuda económica prevista dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género que residen en la comunidad autónoma vasca y que carezcan de suficientes recursos económicos y tengan especiales dificultades para encontrar empleo

de los daños sufridos a nivel físico pero también a nivel autoestima psicológico emocional patrimonial

antes incluso de que el sistema público contemplara algún tipo de respuesta a personas y colectivos en situación de discapacidad exclusión desprotección o dependencia realizando una contribución histórica a la configuración de los actuales sistemas vascos de servicios sociales y de inclusión y empleo entre otros

que combinan la respuesta a las necesidades con la acción transformadora y la colaboración con las instituciones con la capacidad crítica y de propuesta de alternativas el tercer sector social constituye un activo que realiza una contribución diferencial al que la sociedad vasca no puede renunciar nuestra sociedad tiene que hacer frente a problemáticas cada vez más complejas y diversas